que los datos reflejan el fracaso de las políticas de empleo desarrolladas hasta el momento enplegu politiken emaitza prekarietatea izan da egonkortasuna

de estas dimensiones con lo que estamos viviendo y con lo que parece que está por llegar

dos aspectos que para nosotras son fundamentales y que se refieren en primer lugar a la necesidad de asegurar el involucramiento activo de los actores claves

el sector del conocimiento las empresas los sindicatos los y las trabajadoras autónomas el sector financiero las organizaciones de la economía social y solidaria el movimiento feminista las asociaciones de jóvenes

a fin de construir una gobernanza colectiva que exprese la voluntad y la convicción de enfrentar la pandemia del coronavirus y en segundo

de una agenda estratégica para la reconstrucción de la economía en nuevos términos para que no se repita lo anterior

y avanzar hacia una sociedad más justa más igualitaria y más sostenible

un objetivo o una misión común y compartida y una nueva dirección horregatik gure ekimenean epe motz ertain eta luzerako begiradak bere gain hartzen dituen

cuál es la conceptualización del auzolan de este gobierno no cuál es ese modelo de gobernanza colaborativa

porque la práctica cotidiana pues es más del yo mi me conmigo

pero la verdad es que nos cuesta encontrar los espacios los espacios

nos piden que confiemos en que ahora sí esa prioridad por el empleo de calidad es cierta aunque esto ya lo hemos oído antes

repiten el error de marcarse como eje principal la creación del empleo y marcar la calidad de ese empleo como algo transversal

y eso ya lo hemos vivido anteriormente y también conocemos los resultados nos piden

los dos grupos que sostienen al gobierno precisamente en esta materia

en relación al empleo de calidad y no lo cumplieron y nos piden que confiemos aunque observamos discursos en los que nos dicen una cosa y la contraria porque escuchamos decir a la señora mendia que ya no es suficiente con crear empleo sino que ese empleo tiene que tener unas características

que efectivamente el objetivo era el empleo de calidad pero que no se podía prescindir de ningún

y conocemos cuáles son los resultados y no es lo mismo no es lo mismo fomentar la creación del empleo que fomentar

en el primer caso el resultado es más precariedad y en el segundo es devolver el control de sus vidas a los y las trabajadoras

sin saber si van a seguir financiando la precariedad y nos piden que confiemos que esta vez sí van a participar todos los agentes claves que van a buscar esos consensos amplios pero no se nos específica mucho y la verdad es que yo creo que

es mucho pedir desgraciadamente el bagaje y el balance de este gobierno en este sentido

nos genera a nosotros muchas dudas como para hacer un acto de fe de este tamaño

va a haber un acuerdo eso no quiere decir que no haya habido conversaciones muy interesantes también entre nosotras pero como dijo santo tomás ver para creer eskerrik asko

gracias señora presidenta señor lehendakari señorías buenos días a todos

generar empleo de calidad no creo que haya nadie en el mundo que no lo pueda compartir parece un objetivo bien intencionado

y que incide directamente en la vida de los ciudadanos nosotros lógicamente también lo compartimos el problema llega cuando nos planteamos cómo se logra ese objetivo

el estado el gobierno la administración pública la que a costa de los contribuyentes de todos los contribuyentes contrate al máximo número posible de ellos

condiciones laborales posibles y de esta forma todos los ciudadanos nos convertimos en empleadores de unos cuantos privilegiados

seguro que ustedes ya han reconocido enfoque es el clásico y trasnochado enfoque marxista

y que hoy no es abrazado ni siquiera por las pocas dictaduras comunistas que aún quedan en el mundo pero

vemos que otros piensan que se genera empleo de calidad con manifestaciones del gobierno y con la creación de ponencias en el parlamento yo realmente no creo que esto funcione así creo que si nos ponemos serios

el gobierno y las ponencias en el parlamento no generan empleo de calidad alta ni baja por eso no entiendo muy bien el fondo de esta ponencia aunque como he dicho al comienzo comparto con el resto de la humanidad el objetivo de la misma en fin pongámonos serios porque el tema lo merece señores proponentes

por el gobierno y por este y por otros grupos parlamentarios una frase que es creo que meridianamente clara el empleo no lo

el papel del gobierno es generar las condiciones propicias para que se genere empleo y entonces llegamos a la pregunta del millón

hace años que también lo sabemos son los emprendedores los que tienen ideas sobre cómo satisfacer las necesidades actuales de la sociedad

y sacrifican su tiempo su energía su vida para sacarlo adelante por tanto qué tenemos que hacer en euskadi para que haya más empleo de calidad desde luego repito no pedirle al gobierno que haga declaraciones ni crear ponencias en el parlamento sino generar un ecosistema en el que proliferen los emprendedores ayudarles

y generar riqueza para todos y estemos tranquilos que ellos son los primeros que saben

solos que necesitan generar empleo y de la máxima calidad posible porque necesitan contratar a los mejores porque necesitan formarlos porque necesitan desarrollarlos y porque necesitan retenerlos por eso hoy traemos aquí una enmienda

que en vez de hacer manifestaciones ponga en marcha un completo paquete de medidas de apoyo a los emprendedores que les permita generar empleo de calidad incluido entre otras y en realidad son casi a título de ejemplo porque se podrían aportar muchas más ideas

de una ley de emprendimiento en euskadi que fomente el emprendimiento y el autoempleo como palanca de transformación económica y social de la comunidad autónoma

de una ley de segundas oportunidades con el fin

y ahora estamos viendo unos cuantos los autónomos

y les facilitemos el acudir a mecanismos de mediación y arbitraje

la ley concursal es una ayuda para las empresas pero para los autónomos no tanto tercero

coordinado desde spri por ejemplo que acerque a empresas ya instauradas

y startups en proceso incipiente y poder crear sinergias que redunden en manera positiva en toda la sociedad cuarto y podríamos seguir hasta diez pero vamos a dejarlo aquí cuarto creación de un programa de apoyo

con el fin de facilitar el relevo generacional de autónomos que tengan intención de jubilarse

a la siguiente generación y en el caso de que no haya relevo generacional

es decir repetimos el empleo de calidad lo generan los que siempre generan empleo de calidad los emprendedores y por lo tanto lo mejor que podemos hacer para que nuestros empleo sea de la máxima calidad
fomentar apoyar a los emprendedores que tenemos en el país vasco gracias eskerrik asko gil jauna euskal sozialistak

muchas gracias señora presidenta yo creo que hay un punto

y es que compartimos todos que el objetivo en el ámbito del empleo debe ser precisamente

sea de calidad y creo que también compartimos que ese objetivo es un objetivo transversal es decir que tiene que ser compartido por todas las instituciones

y en lo que nos toca como gobierno vasco que ese sea un objetivo que se desarrolle en todas y cada una de las políticas públicas de este gobierno y yo creo que es un buen punto de partida y de hecho creo que es un ambicioso punto de partida porque con la que está cayendo

simplemente con crear empleo de cualquier tipo y sin embargo en una situación como la actual en una crisis sanitaria que ya es una crisis económica y social hoy estamos diciendo

que ese empleo que el objetivo tiene que ser crear empleo decente y empleo de calidad y por eso digo que me parece un reto que es ambicioso porque

nosotros décimos que el camino es otro y que la crisis no puede ser una excusa para andar en caminos hacia la precarización en la interpelación la señora nos decía que era el empleo de calidad para eh bildu y yo le puedo decir señor

que podemos suscribir esa definición perfectamente la podemos suscribir y como bien sabe empleo de calidad

la oit define el trabajo decente y nos dice que significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo la seguridad en el lugar de trabajo la protección social de las familias las mejores perspectivas del desarrollo personal e integración social

opiniones se organicen y participen y por supuesto la igualdad de oportunidades y de trato

el trabajo decente y los cuatro pilares del programa de trabajo de la oit que son la creación de empleo protección social derechos en el trabajo y diálogo social conformaron la parte básica los elementos centrales de la agenda dos mil treinta del desarrollo

aprobada por las naciones unidas el objetivo ocho concretamente nos habla de promover el crecimiento económico sostenido inclusivo sostenible el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y a mí me parece muy importante ese verbo

promover que es impulsar la realización de algo es decir nos lleva a abandonar el marco teórico para ir a los hechos para bajar

a asumir ese reto como propio y yo quiero decir aquí que este gobierno

como propio en toda su extensión y en el ámbito de todas sus competencias

es verdad que el gobierno no es el principal generador de empleo pero también dijo que los gobiernos crean las condiciones para que las empresas generen empleo y que además los gobiernos establecen el marco y las garantías para que ese empleo sea

verano partido socialista y partido nacionalista vasco ambos fijamos claramente en el acuerdo de gobierno como se puede ver un compromiso evidente

decente nuestro compromiso además como socialistas vascos en favor del empleo decente y de calidad es contundente nadie puede entender una casualidad que precisamente nuestra secretaría general la vicelehendakari idoia mendia asuma

el reto de liderar este ámbito dentro del gobierno como todos ustedes conocen en el plan de gobierno que ha sido remitido a esta cámara se contempla un buen número de iniciativas vinculadas precisamente a ese objetivo ocho

económica y de empleo de euskadi que se enmarca en el ámbito de crecimiento sostenible y se compromete a dar respuestas a las tres transiciones para transformar euskadi construir una euskadi más verde más digital y más inclusiva y este

tiene una prioridad el empleo de calidad un programa que se ha contrastado con la mesa de diálogo social y los agentes sociales y económicos de la mesa socioeconómica con ayuntamientos con diputaciones forales y que se configura como un programa abierto y flexible y sobre el que se procederá a contrastar su evolución

periódicamente y en ese mismo sentido tal y como apuntó la vicelehendakari idoia mendia está comprometida la nueva estrategia de empleo dos mil veinte dos mil treinta

y vino dando buenos resultados hasta la llegada de la pandemia contando con los agentes socio económicos tendrá como objetivo precisamente introducir una visión de país

con salarios dignos con derechos laborales y además desde ese ámbito transversal como un eje transversal de las políticas públicas de todas las instituciones vascas y yo decía que era el momento de concretar y en el punto tercero de nuestra enmienda concretamos esos factores determinantes que entendemos que deben ser incluidos

porque yo coincido que más allá de hacer declaraciones genéricas creemos que es el momento de concretar y en esa enmienda hablamos de innovación

hablamos de protección de los derechos laborales de colaboración institucional de estabilidad laboral y competitividad empresarial de la reducción de la brecha salarial

la flexibilidad horaria la reducción de la temporalidad la disminución de la parcialidad la formación permanente la seguridad y la salud laboral

participativo de empresa y en realidad podríamos incluir muchas más cosas los doce compromisos y treinta y siete iniciativas recogidas en el propio programa de gobierno relativas al epígrafe de empleo y tal y como le decía al principio de la intervención

el otro día de lo que eh bildu consideraba que era empleo de calidad nos vemos reflejados y vemos reflejadas precisamente estas cuestiones que hemos

muy interesantes sobre las cuestiones de fondo y dónde ha estado el punto que no ha permitido del acuerdo en la metodología

es la hora de actuar y existe un compromiso claro y público de este gobierno con el empleo decente con el empleo de calidad y una firme apuesta para llevarlo a cabo

y nosotros estamos dispuestos a recibir aportaciones a la hoja de ruta pero señora kortajarena

la hoja de ruta la metodología que plantea es cambiar la hoja de ruta de este gobierno y solo hay que ver en las cuestiones de fondo que si nos ponemos a hablar de lo que verdaderamente tiene que recogerse vamos a estar bastante de acuerdo por lo tanto yo creo que tenemos puntos para explorar

ningún acto de fe permítame la maldad usted nos pide un acto de fe haciendo entender que eh bildu

la señora vicelehendakari nosotros estamos dispuestos a recibir aportaciones pero el gobierno tiene que gobernar entonces no es un acto de fe estamos empeñados
en esto y estoy seguro de que podremos abordar acuerdos a lo largo de la legislatura nada más y muchas gracias eskerrik asko rico jauna

andrea y veo las ideas básicas de su discurso entonces en el momento de la interpelación y hoy nos decía y nos dice debemos hablar con tranquilidad y yo añadiría con este tono

y no es una cita es una relación de ideas empleo sin exclusión con condiciones justas y adecuadas con protección y seguridad vital con oportunidades

la participación de la persona trabajadora que busca un reparto de riqueza justo y equitativo que reduce el impacto medioambiental creo que no me he dejado ninguna de las ideas de su definición pues sí estamos hablando de lo mismo incluso podríamos ampliar la definición entiendo nosotros lo hemos hecho como decía el señor rico

y además entiendo que es una definición abierta que otras personas pueden completar yo estoy de acuerdo con su definición usted está de acuerdo con nuestra ampliación estaría interesado en que nos contestase a esa pregunta además nos decía

también y también nos decía el futuro no parece nada fácil con muchos riesgos para el empleo de calidad de acuerdo cuatro de acuerdo seguidos

entre lo que la sailburu dice y lo que dicen otros miembros del gobierno y hablaba del lehendakari y lo que dice el acuerdo de gobierno pero no nos concreta esas diferencias es su teoría de la enmienda a la totalidad que hoy también ha hecho referencia yo buceo en el acuerdo y en el programa y no veo esas diferencias le pediría que me diese luz sobre esa cuestión

como usted lo hace no puedo estar de acuerdo usted pasa a hablar posteriormente de intenciones objetivos compromisos de la anterior legislatura y

y nos dice no me quiero enredar en los datos pero la política de empleo hasta ahora ha sido un fracaso un fracaso eso nos dice hoy también lo ha dicho

hacer un avance en busca de un acuerdo pero se encuentra con una dificultad que diga no me quiero enredar en esto en estos datos en este detalle en este capítulo en este

e intenta avanzar en el acuerdo pero esta práctica suya de decir no me quiero enredar en los datos no hacer análisis ninguno y sacar una conclusión fracaso

además tampoco ayuda a acordar todo lo contrario bloquea el acuerdo usted actúa teniendo

prefiero que se enreden los datos siéndole sincero es algo bastante más riguroso en cualquier caso le agradezco el tono

sailburu le contestó haciendo un riguroso ejercicio de análisis de datos a mi juicio análisis de datos cuantitativos y cualitativos vinculados al empleo de calidad

pero a diferencia de su planteamiento y teniendo buenos datos en los que apoyarse dijo

aún tenemos asignaturas pendientes no reconoció el fracaso

sin triunfalismos pero sin catastrofismos un análisis riguroso a mi juicio realista y después del análisis un claro planteamiento político por encima de las diferencias seguir buscando el acuerdo

un nuevo ejercicio de la doctrina del paréntesis que no podemos compartir yo no entiendo su doctrina del paréntesis le voy a decir la verdad no lo entiendo

ya la compartiremos más a ver si soy capaz de entenderla no la entiendo pero me quedo con el concepto doctrina

eztabaida honetan nosotros nos presentamos a unas elecciones con un programa electoral una de las prioridades de ese programa electoral y es público es el empleo de calidad ese programa electoral nos compromete con la ciudadanía vasca

después de las elecciones llegamos a un acuerdo con el partido socialista que también recogía ampliamente el empleo de calidad en su programa como ha dicho el señor rico nosotros entendemos que ese acuerdo que firmamos no contradice ni vulnera nuestro

al contrario entendemos que lo complementa el partido socialista también se ha pronunciado en este sentido el acuerdo de gobierno se materializa en el programa de gobierno con compromisos e iniciativas más detalladas un contrato con la ciudadanía

deben recogerse las aportaciones pues sí es lo que se está diciendo para ello planteamos una metodología diálogo

diálogo sin exclusiones diálogo con voluntad de acuerdo esta es una cuestión metodológica hoy hablamos de metodología este es un debate sobre metodología esta es una cuestión metodológica y es una cuestión de metodología hacia adelante

y nosotros también tenemos un planteamiento metodológico también de base de reconocimiento estamos avanzando sobre bases que ya existen

a retos como el nuestro y que dieron lo mejor de su saber y de su hacer personas que nos han cedido sus herramientas y un proyecto de futuro

usted ustedes nos plantean una doctrina una doctrina con hasta ahora a mi modo de ver tres principios de actuación y estoy refiriéndome al ámbito del empleo

de contrato con la ciudadanía ustedes ponen en marcha la que yo llamaría

ya le explicó la sailburu que no presenta enmiendas a la totalidad ella su partido ya era parte de este gobierno en la anterior legislatura usted

frente a nuestro planteamiento de diálogo con voluntad de acuerdo ustedes ponen en marcha el principio de actuación del todo o nada

mencionar ya le decía que hace unos días

ustedes en este caso usted señora kortajarena pone en marcha el principio de actuación de tabula rasa

antes de llegar nosotros refiriéndome a ustedes este último principio de actuación es el que nos presentan en el día de hoy a debate con ello señora kortajarena ya tenemos su trilogía completa parafraseándole a usted su doctrina

el ámbito del empleo tampoco es una doctrina tan novedosa son principios de actuación que conocemos del pasado tal vez sí tenga una novedad

algo que envuelve su doctrina con delicadeza el tono yo sinceramente se lo agradezco bien

nosotros creemos que hay que enfocar el futuro desde la colaboración y no desde la confrontación vienen tiempos complicados estamos ya viviendo tiempos complicados sería un activo el poder contar con su participación

y con la de todos los agentes económicos y sociales del país a todos nos corresponde hacer un esfuerzo mayor a las administraciones por supuesto pero también

queremos volver a situar el paro por debajo del diez por ciento lo hemos dicho una y otra vez es cierto pero con la misma insistencia

con menos temporalidad con las características que hemos recogido en nuestro texto de enmienda y no son palabras de trazo grueso de brocha gorda son compromisos que

han suscrito con la sociedad vasca y son compromisos que se van a cumplir pueden quedarse otra vez en una esquina con los brazos cruzados o pueden colaborar

hemos atravesado por momentos complicados en el pasado con crisis y altas tasas de paro y supimos responder y ahora

desde vox trabajamos para que empresarios autónomos y trabajadores vivan en un entorno de bienestar y de complementación a diferencia de ustedes a diferencia de la izquierda nosotros no partimos de principios falsos nosotros sostenemos que

tampoco creemos que todos los trabajadores sean santos las relaciones laborales son un todo complejo difícil de generalizar hay de todo en la viña del señor

pero también hemos oído verdades tanto en la interpelación del otro día como en las diferentes exposiciones de hoy

son muchas las familias que no llegan a fin de mes y los bancos de alimentos y similares se han visto desbordados desde el inicio de la pandemia ahora bien una mesa interdepartamental y ponencias para llegar a quién no hay informes suficientes al respecto

no hay una patronal que expone con rigor la realidad de nuestras empresas y sus problemas desde vox siempre seguimos

ya hay organizaciones que estudian el tema ya sabemos todos cuáles son los problemas y unos y otros nos ponen sobre la mesa soluciones la tarea ahora es del parlamento es de los políticos señores de bildu ofrezcan sus medidas para el empleo de calidad directamente su nacionalismo a veces les ciega

lab que decía hace unos días que quería hacer obligatorio

el empleo solo es de calidad si es euskaldun hay muchas diferencias entre las propuestas de vox y las de bildu ustedes solo piensan en los trabajadores vascos ustedes excluyen

vascos y en cambio nos preocupamos nosotros por todos los trabajadores lo dijimos el otro día en la comisión de trabajo y lo vuelvo a repetir ahora en la situación actual el objetivo es salvar empleo debemos tomar medidas con cierta prisa

tenemos que tomar medidas para salvar el trabajo de hoy y poder asentar las bases del fomento del empleo decente en la izquierda siempre dicen lo mismo

generan unas condiciones imposibles que en definitiva en un mundo global hacen menos competitivas a nuestras empresas ahora resulta que las agendas esa que quieren crear va a salvar el mundo son los reyes de la burocracia del moverlo todo para que nada cambie

pero qué hacer con las pequeñas empresas qué hacemos con las tiendas de barrio es muy difícil solicitar e instar a los ciudadanos que no consuman en amazon

no podremos competir no hay valor añadido que valga en este punto en el comercio o se juega con las mismas armas o no hay nada que hacer en resumen desde vox votaremos
no en vox sabemos que los trabajadores no quieren más brindis al sol quieren medidas y las quieren ya muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

egun on denoi legebiltzarkideok garantizar que los empleos en euskadi sean empleos de calidad es desde luego

izquierda unida por esa razón aunque tenemos un diagnóstico y una propuesta programática trabajada además con diferentes actores al respecto especialmente aquellos que representan a las y los trabajadores y a los autónomos

la constitución de la ponencia que nos propone hoy el grupo eh bildu con el fin de luchar contra la precariedad generalizada y por su erradicación más aún en estos tiempos de pandemia e incertidumbre es necesario desarrollar medidas

y corre el riesgo de ampliarse a mayor parte aún de la población

por esta misma razón nuestro grupo registró una iniciativa al respecto hace

a debate para intentar consensuar en ese caso algunas acciones y medidas concretas nosotros vamos a respaldar por lo tanto la iniciativa de la señora

porque creemos que desarrollar una ponencia sobre el impulso del empleo de calidad en el seno del parlamento vasco es como mínimo dar un papel relevante

es prioritaria y fundamental es cierto que algunas de las cosas que podamos escuchar en esa ponencia de la mano de diferentes agentes ya las conozcamos

en diferentes formatos incluidas comparecencias parlamentarias en esta misma casa pero otorgar la centralidad que le da una ponencia específica al empleo de calidad nos parece algo más que pertinente y encaja desde luego en la importancia que mi grupo quiere dar a esta cuestión

a respaldar la iniciativa una iniciativa que además nosotros pensamos que no impide ni es contradictoria con que el gobierno empiece a implementar sus planes el acuerdo de gobierno al que ha hecho referencia tanto el señor aiartza como el

esta iniciativa que nos parece una buena idea porque además tenemos claro que la precariedad laboral ha aumentado durante la última década de manera exponencial

en nuestro entorno encontramos situaciones laborales que distan mucho de asemejarse a unas condiciones decentes este mismo lunes la asociación malen etxea denunciaba la situación del colectivo de las trabajadoras de hogar y trabajadoras de cuidados en la comisión de empleo

mujeres que realizan una labor veinticuatro horas al día trescientos sesenta y cinco días al año prácticamente pero la precariedad recorre casi todos los sectores en unos con más crudeza es verdad que en otros

con un rasgo común un predominante rostro de mujer si estamos hablando de la necesidad de impulsar de garantizar el empleo de calidad es porque la precariedad laboral es la norma mujeres que a ritmo frenético recorren en autobús

porque tienen que cumplir con todos los clientes que ha conseguido la empresa la cual

mínimo imprescindible transportistas y repartidores con jornadas sin límite que ponen la herramienta adelantan el pago del gasoil o se comen multas de aparcamiento inevitables

obligada profesionales de la hostelería que no han conocido un contrato indefinido en la vida y con jornadas fragmentadas a cachos

el día completo en el trabajo empleadas de supermercado multicategoría lo mismo en la caja que reponer pasar la máquina fregadora

operarios que aterrizan mediante empresas de trabajo temporal en una cadena de fabricación de pomos de puertas hoy

son solo algunos ejemplos y no son situaciones excepcionales en euskadi

se trata de empleos y condiciones laborales extendidas y habituales también

ejemplos que en nuestra opinión tienen responsables hay que decirlo y señalarlo para abordar el problema porque la precariedad laboral es producto de intereses concretos las políticas que busquen garantizar la calidad en los empleos no pueden en nuestra opinión negar esto ni de manera deliberada ni de manera ingenua y este es para nosotros un punto de partida la precariedad laboral

atmosféricos incide en muchas cuestiones pero la precariedad laboral la pauperización de las condiciones de trabajo y vida de las y los trabajadores

del beneficio del capital no es cierto es demagógico afirmar que grupos como el nuestro por ejemplo creen que todos los empresarios

simplemente responden a intereses diferentes eso es lo que décimos y eso es

empleados públicos y así es como se produce lo que llamamos precariedad laboral como digo no aparece por ciencia infusa la contradicción capital trabajo y más allá la contradicción capital vida sigue siendo la expresión máxima de las limitaciones y barbaries

nuestra sociedad en la última década en un modelo capitalista que presenta evidentes síntomas de crisis orgánica

más agresivas para asegurar una tasa de ganancia que necesariamente deben garantizar para seguir sosteniendo los procesos de acumulación de riquezas no podemos obviar esas dinámicas cuando hablamos de empleo de calidad esas dinámicas hacen que las contradicciones del capital se agudicen y que las desigualdades se ensanchen la ofensiva contra la clase trabajadora es una ofensiva en forma de reducción de sueldos

de facilitamiento y abaratamiento del despido de ataques contra la negociación colectiva y en definitiva del debilitamiento del trabajo frente al capital

reformas que han ido liquidando poco a poco derechos y debilitando a la clase trabajadora garantizar un modelo de relaciones laborales que permita a los sindicatos jugar su papel es desde luego

de coalición en el estado del que saben que formamos parte y que se debe

primero revertiendo la reforma laboral del partido popular y luego avanzando en un estatuto de los trabajadores que defienda con eficacia a la clase trabajadora pero junto a los cambios legislativos

pasa por otras políticas de empleo en euskadi y por otras políticas de desarrollo económico en euskadi además pensamos que junto a la creación del empleo de calidad

el mensaje a quienes en estos momentos tienen un trabajo precario no puede ser solo que las políticas van a ir dirigidas a crear empleos de calidad

sean dignos sean los que sean y pertenezcan al sector que pertenezcan hostelería limpieza cuidados y otros

estos empleos y no se debe aceptar desde luego nosotros no vamos a aceptar que tengan que ser precarios o sí hay que luchar y trabajar por erradicar la precariedad laboral en todos los sectores y ahí tiene un papel fundamental la inspección de trabajo osalan y el propio departamento de empleo del gobierno vasco pero también nuestras administraciones públicas en todos los niveles que además contratan subcontratan y adjudican multitud de servicios en sectores muchas veces precarios y que por lo tanto tienen un papel que jugar también

que tienen que jugar diferentes actores por eso nosotros ponemos en valor

que muchos actores que tienen que jugar en euskadi un papel en esta materia pueda jugarlo en este parlamento de la mano de los grupos parlamentarios

obligan a desarrollar políticas concretas con un objetivo con un empleo solo sea tal si se desarrolla en condiciones realmente dignas nosotros no aceptamos no vamos a aceptar jamás la consigna se utiliza de mejor un mal empleo que nada quisiera hacer mención a algunas reflexiones que se han vertido

que el empleo de calidad lo generan los emprendedores

y el empleo precario quién lo genera entonces no es una cuestión solo de quién genera el empleo las administraciones públicas tienen un papel fundamental en la generación del empleo de calidad los emprendedores en la generación de la calidad del empleo pero si

la expresión que usted ha utilizado a que los emprendedores son exclusivamente los que generan empleo de calidad les tendremos que otorgar algo que nosotros no estamos de acuerdo son los emprendedores los que generan también el empleo precario y no compartimos nosotros ese saco que parecen utilizar cuando hablan de emprendedores donde parece que entra en el mismo saco

un ejemplo para nosotros el primero es un trabajador bajo la figura de autónomo el segundo es un propietario

por no haberme querido enredar en los datos realmente yo no sé si

lo que ha hecho hoy es algo así como si no sé no me acuerdo

hemos discutido infinidad de veces infinidad de veces sobre la calidad del empleo y sobre los datos con rigor

en este sentido hemos hablado también de los resultados de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales y hemos hablado de informes como el de foessa e incluso de un informe especial que foessa realizó en relación a la pérdida

hemos hablado en infinidad de ocasiones y hemos puesto datos encima de la mesa

son los de algunos los de las propias encuestas del gobierno vasco y hemos discutido sobre ellos incluso en ocasiones hemos llegado a acuerdos

como las que estamos discutiendo hoy y esos acuerdos no se han cumplido

es más cuando se presentó en este parlamento el anterior plan de empleo

no presentaba ningún indicador para medir la calidad del empleo que se iba a generar

todos esos indicadores y para redireccionar ese plan en la dirección del empleo de calidad y aquello tampoco se hizo con lo cual

que hay que recordar porque parece que no se recuerdan porque desde luego el empleo de calidad o hablar del empleo de calidad

de nuestra mano pero tampoco es que los resultados en esta materia de todas las voluntades que ustedes nos han manifestado aquí sean para muchas florituras porque la precariedad está instalada como demuestran los datos en nuestra sociedad lo

y yo voy a mencionar una muy concreta y es que tenemos una generación de jóvenes

uno de los objetivos principales de la oit es que los trabajadores y las trabajadoras recuperen recuperen el control sobre sus vidas y eso es

venimos a plantear con iniciativas como estas que desde luego creo que tienen poco de confrontativas y tienen bastante de tender manos y

generar sinergias y de generar también confianzas pero bueno pues cada uno

ver para creer que hay coincidencias eta zenbait kontuetan ados egon gaitezkeela

nire taldekideak esaten duen gauza bat este gobierno vence hoy

bueno estamos de acuerdo todos en que hay que defender impulsar y proteger el empleo de calidad

y también parece que estamos de acuerdo todos en que hay que perseguir el empleo que hemos llamado precario el empleo de no calidad el empleo que entiendo que es el empleo ilegal

que es el empleo irregular que es el empleo fraudulento nuestra sociedad tiene mecanismos actuales para perseguir

que saltan la ley tenemos inspecciones de trabajo tenemos sindicatos etcétera y estamos completamente de acuerdo en que

hay sectores que efectivamente no disponen de la fuerza suficiente como para defender

en el empleo y que efectivamente la administración tiene que velar por sus intereses estamos hablando entiendo de esto o estamos hablando de endurecer las condiciones para acceder a un trabajo mínimo que es un debate que puede ser interesante

son bajos tenemos unos contratos concretos

que tuviesemos un contrato único por ejemplo con otras garantías no sé pero lo que no puede ser es que cuando termine este debate

que todos conocemos y que todos lamentamos y que es verdad que existen pues sigan igual es decir no hayan sentido ni un rayo de esperanza después de este debate porque todo esto se ha quedado

en declaraciones altisonantes tales como tenemos que frenar la ofensiva contra la clase trabajadora yo

y ponernos a trabajar en cosas concretas

hemos hecho un listado de propuestas muy concretas les animamos a que las apoyen para que podamos empezar

en la que efectivamente el nivel de calidad del empleo mejore y eso lo genera una economía más activa más rica donde efectivamente hay menos empleos precarios y dando por supuesto que todos sean absolutamente legales y si no que actúe la ley

que tenemos es decir estaría bien que este debate terminase en

que están efectivamente en esa situación que es muy lamentable y que además

que puedan tener alguna alternativa pronto muchas gracias eskerrik asko gil jauna euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

y además creo que cuando el debate se da en este tipo de tono suele obedecer a circunstancias como que

y yo me quiero quedar con eso y de verdad que creo que esas coincidencias una vez que pase un determinado tiempo

yo creo que vamos a poder abordar es importante

para saber a dónde vamos saber de dónde venimos y puede haber lecturas diferentes nosotros tenemos una lectura clara y no la ocultamos

últimos tiempos se han hecho cosas que dieron buenos resultados antes de la pandemia

los indicadores económicos estaban en positivo llegó la pandemia y eso pues

pero tenemos un trabajo hecho hay unas bases sólidas construidas y esas también hay que aprovecharlas y lo contrario sería un error absolutamente quedan asignaturas pendientes sí lo dijo la vicelehendakari el otro día en su respuesta a la interpelación

a asignaturas pendientes está todo lo que hemos planteado la metodología que usted

es lo que hoy nos ha separado pero vuelvo a repetir el ámbito de fondo es muy compartible y eso es lo que nosotros

que explorar nos separa la metodología porque no es verdad que hacer un ámbito tan

la expresión dé un carácter más democrático o menos democrático a las decisiones de hecho

ustedes han compartido con nosotros en el gobierno de españa la adopción de decisiones como por ejemplo que han permitido llevar a cabo el escudo social

sobre reflexiones que como señalaba el señor hernández ya hemos venido haciendo durante muchísimos años y en este momento yo creo que es el momento de tomar decisiones y este gobierno lo recordaba la señora vicelehendakari tiene un compromiso claro con el empleo de calidad y los instrumentos son

del gobierno la innovación porque estamos en un momento inédito que necesita respuestas nuevas

a un empleo de calidad y los jóvenes el diálogo social y la concertación de las políticas públicas de empleo la salud laboral porque no hay empleo decente sin garantías de salud el refuerzo de la inspección laboral yo quiero recordar en esas herramientas que han funcionado

regularizados en la pasada legislatura la transformación del sistema público de empleo que haga de lanbide un instrumento útil para la formación de trabajadores sean activos u ocupados la nueva estrategia de empleo dos mil veinte dos mil treinta que recogemos esos

la colaboración institucional para llegar a esa transversalidad y la estabilidad y la serenidad política no les estamos pidiendo un acto de fe de verdad no cuestiones concretas en las que creemos que se puede aportar evidentemente

y le voy a decir señora kortajarena que este gobierno no tiene la actitud de vencer

otra cosa es que usted nos traiga aquí una iniciativa para intentar vencer al gobierno no puede no salen los números

que asumir y evidentemente este gobierno los dos grupos que apoyan al gobierno cuando se le plantea la oportunidad de ratificar la hoja de ruta

que nuestra enmienda no la vamos a desaprovechar evidentemente pero nuestra actitud no es la de vencer es la de convencer y

esta materia y yo creo que en ese momento será una oportunidad también para intentar avanzar en algunos acuerdos también porque

con el compromiso hacia el empleo decente es un elemento claro de coincidencia y de consenso
que tendremos que abordar nada más y muchas gracias eskerrik asko rico jauna

para pedirle básicamente disculpas eh usted nos propone hacer o plantear cuestiones más concretas entrar al detalle de lo concreto y tal y yo realmente siento me parecen interesantes esas aportaciones como me parecen muy interesantes también las aportaciones del señor hernández pero siento que la realidad del debate nos haya llevado a cuestiones

y es en lo que yo me he centrado hoy más

al señor otero ya existían cosas antes del señor otero también cuando habla de que yo le he acusado de falta de rigor

sin ajustarse a un análisis suficiente ha calificado todo de fracaso eso me parece falta de rigor no le acuso me parece

corrección de las contrataciones desde la inspección de trabajo yo creo que no es un fracaso y un día lo reivindicaba como éxito como éxito además de ese

que hicieron un esfuerzo excepcional pero no digo es un éxito

de la sailburu estamos trabajando en ello es casi nuestra obsesión pero tenemos asignaturas pendientes parece que le he decepcionado bueno usted también me ha decepcionado a mí un poquito en el tono

correctísimo y así me gustan los debates pero sí me ha decepcionado

otro tema que nos había traído el señor hernández una proposición no de ley sobre

trabajo decente como dice el objetivo de desarrollo sostenible trabajo decente usted nos hablaba el

yo creo que podríamos haber esperado una semana no y haber acumulado las dos iniciativas

y nosotros lo hemos hecho con ese respeto hemos enmendado con textos diferentes me parece que hubiese encajado más con su planteamiento con el planteamiento que nos traslada de hacer planteamientos globales de hablar con tranquilidad de respeto hacia todos se ve que no

pero me hubiese parecido mucho más interesante y además estadísticamente se acuerdan más

en las iniciativas acumulados y luego tengo otra pequeña decepción vinculada al objeto de ese debate

el reconocimiento al trabajo realizado anteriormente por otras personas a la forma de referirse a esto en la interpelación habló algo

del pasado óxidos de los pasados en el camino del óxido

y para mí esta sala representa por un lado nuestra historia reciente esta parte

y por otro esos trozos de manera más oscuros en izaro

más nueva representan nuestra historia más lejana usted se sienta y yo me siento en un escaño de madera y hacemos nuestro trabajo desde esos escaños gracias al trabajo de personas que nos precedieron también y yo no voy a renunciar a eso

sin enredarme yo le planteo una oferta en tres partes colaboración diálogo con voluntad de acuerdo y reconocimiento al trabajo realizado por quienes nos precedieron y voy a utilizar

utilizar también usted tengo la sensación que es una expresión que me gusta mucho tengo la sensación yo en este momento tengo la sensación de que van a renunciar o que no van a aceptar

y tengo la sensación de que pueden llegar tarde otra vez aunque espero equivocarme eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

bien nosotros no nos corresponde a nosotros defender

con especial énfasis la iniciativa que trae eh bildu porque creo que la señora

es más que suficiente para defender sus iniciativas y así lo ha hecho pero desde luego no compartimos

para vencer al gobierno vasco a nosotros desde luego no nos da esa impresión por una razón yo creo que la he mencionado antes y si no

de crear una ponencia en este parlamento no impide que el departamento siga adelante con lo que tiene planificado con lo que nos expuso

con el acuerdo de gobierno que ya nos han explicado no es incompatible para nada

que no es incompatible con los planteamientos del gobierno y de los grupos que sustentan al gobierno pues difícilmente me parece que sea explicable que es una iniciativa que viene a vencer al gobierno

señor rico que yo creo que usted ha dicho que yo creo que es más bien un desliz porque yo creo que usted no piensa eso usted ha dicho que esa ponencia

sea del tipo que sea esté usted de acuerdo o no con la creación de esa ponencia no es un proceso asambleario es una ponencia en el parlamento vasco donde efectivamente

dar su opinión los actores que los grupos parlamentarios consideremos que tienen algo que decir respecto a esta cuestión

de un proceso asambleario yo creo que es más bien

cuando ha dicho eso decía otra cosa que ustedes y nosotros no sé si

pero ha dicho de alguna manera que estamos obligados a ponernos de acuerdo

pero no solo porque tengamos en este momento un gobierno compartido en el estado

de empleo de calidad es bueno que nos pongamos de acuerdo ustedes y nosotros ustedes nosotros y el resto de grupos nosotros

entonces yo no tengo ningún problema en acordar medidas que nuestro grupo considere que son buenas para el empleo de calidad

incluso con el señor gil aunque partamos de conceptos

confrontados pero sí que hay una cosa que desde luego nosotros no compartimos de lo que ha expuesto en su segunda intervención porque además creemos que es que no es así usted ha descrito la precariedad en el empleo la ha circunscrito solamente

y esto no es así en nuestra realidad hay multitud multitud de empleos perfectamente legales perfectamente legales en condiciones donde un inspector de trabajo no podría hacer nada porque cumplen la legalidad y son empleos precarios y en condiciones precarias muchísimos de ellos por supuesto luego están las violaciones de la legalidad los abusos

que es lo primero que hay que atajar y siempre hemos hecho mucho hincapié en que no tenemos los recursos suficientes

tanto con la inspección de trabajo como con nuevas fórmulas de colaboración más allá de la inspección de trabajo para perseguir el fraude en materia laboral que está muy extendido que es verdad pero no podemos circunscribir la precariedad del empleo solamente a las situaciones de fraude

están los sindicatos pero que también es verdad que los sindicatos no pueden llegar

a muchas empresas y simplemente hacer una referencia hombre yo he hecho

una reflexión política ideológica para introducir nuestro pensamiento sobre esta cuestión a usted le ha parecido que parte de ella se compone

hablando en pleno año dos mil veinte en el parlamento vasco en un debate sobre una ponencia para crear empleo de calidad le han faltado treinta segundos de su intervención para ponerse hablar de la unión soviética de las dictaduras comunistas etcétera que bueno a mí me encanta me encanta escuchar la palabra unión soviética en este parlamento

no ha sido de frases altisonantes sino de explicar la concepción ideológica que hay detrás de mi grupo a la hora de abordar estos temas

ezta bueno a ver vamos a volver a votar la votación ya que

de la señora larrea y del señor gordillo el señor

presencia en este pleno yo tenía delegado sí con voto delegado

carmelok bale pues carmelo gil no va a activar

gracias señora presidenta lehendakari consejera señorías egun on bien el pasado día dieciséis de octubre interpelábamos a la señora consejera de salud en relación con la necesidad de

en las necesidades sanitarias y de vigilancia y control de la salud que estamos viviendo este año y que con toda seguridad

viviendo también un tiempo esperemos que el más breve posible

en esta situación hoy quiero decir que en relación con el propósito de nuestra moción y de nuestro grupo en relación con dar pasos

la moción presentada consecuencia de la interpelación

nos referíamos en aquella interpelación a que los expertos foros de expertos de diferentes sitios y partes del mundo en salud pública

habían estudiado la situación sobre todo de los sistemas sanitarios

y hacían un hincapié permanente y hacen un constante hincapié en la importancia de que

la atención primaria sea reforzada entre otras cuestiones también la salud pública y en relación a la atención primaria que se recoge también en esta moción

y es esencial para la contención del virus de eso también supongo que seguiremos hablando bastante en este parlamento pero bueno en el marco de la salud pública y la atención primaria

ya se habían manifestado de una manera contundente haciendo instancias a los gobiernos a los gobiernos en el caso

el reforzamiento de esas partidas y de esos esfuerzos

mi grupo popular ciudadanos presentó esta interpelación también hace tiempo antes

presentación de los presupuestos y

y era urgente que antes de la presentación de esos presupuestos para dos mil veintiuno en la cámara se pudiera hacer una reflexión sobre el reforzamiento de partidas presupuestarias en el ámbito de la salud pública y que el

algo que va a dar una sensación una imagen positiva y de esfuerzo de esta cámara en relación con seguir abordando los problemas que se generan en estos momentos

nosotros nos centrábamos en el programa de salud pública y era una consideración compartida entre el mundo científico lo hemos visto en diferentes ámbitos como decía y los expertos en la materia de que era necesario pues incrementar esos esfuerzos en lo que

la atención primaria también en el próximo posibilidad del sistema

que se han abordado desde luego

esas reflexiones que se hacían foros celebrados recientemente incluso hemos visto declaraciones muy interesantes y muy oportunas de quien fue también

en relación con cuestiones importantes que tienen que tener trascendencia y que tienen que suponer que es el señor

experto también en salud pública pues que se ha pronunciado en diferentes momentos y en el marco también

vuelvo a decir que marcaron la necesidad de este pronunciamiento las conclusiones en concreto de un foro celebrado hace tres meses sobre salud pública y vacunaciones en el que participaron

sociedades médicas y científicas asociaciones de pacientes empresas biotecnológicas especialistas en enfermería o analistas del sistema sanitario yo creo que fue un foro con muchas conclusiones muy interesantes de carácter general

yo creo que esas conclusiones eran muy claras la pandemia

de que esta disciplina sea reforzada o la inversión en salud pública queda muchas veces relegada en un segundo plano el otro día hablábamos de que la salud pública bueno sus presupuestos

que parecían importantes sobre todo con la visión que tenemos ahora quizá en los presupuestos dos mil diecinueve no se contemplaban pero lógicamente pues ahora hay que verlo de otra manera y en ese sentido decían estos expertos que

esta crisis sanitaria que vivimos invertir en salud pública no es una opción sino que es una obligación

las conclusiones vuelvo a repetir también incidían en el reforzamiento de la atención primaria

al sistema sanitario de la población y es esencial para esa contención de la pandemia eso también se ha recogido en la enmienda de transacción nosotros ya hemos dicho que tenemos que hacer un esfuerzo todos la sociedad nos tiene que ver

un esfuerzo común en articular herramientas que sirvan a la sociedad que fortalezcan un sistema hoy tocado por la pandemia entendemos que ese es el propósito de la moción que presentamos y de la enmienda de transacción que hemos firmado

del sistema sanitario y de salud nosotros queremos ese compromiso

no vamos a entrar a cuantificar pero sí que queremos ese compromiso de reforzamiento y que sea claro y que efectivamente ese aumento presupuestario demuestre que se pueden hacer más cosas hemos

que dice que hay que incorporar en los próximos presupuestos los compromisos adquiridos en el programa de gobierno dos mil veinticuatro relativos a reforzar la atención primaria y avanzando en la integración

eso fue ya se presentó por parte de la consejera por parte del programa de gobierno iremos viendo todavía faltará tiempo para esa la aprobación de esa ley

invirtiendo y hay que seguir apostando por programas de salud pública se refería también a ese esfuerzo

primaria que lo necesiten bueno es un elemento esencial tanto las inversiones de nueva planta como las reformas o remodelaciones de centros sanitarios es

apoyando la atención primaria y lógicamente eso tiene que formar parte de esa prioridad y nosotros también decíamos en ese primer punto que se reforzarán los programas de salud pública referidos a las actuaciones de control y vigilancia epidemiológica

que ese refuerzo era necesario y en esas claves también es en las que se pronunciaban los expertos a los que me he referido y en un segundo punto pues hablamos de

original de los grupos que apoyan al gobierno bien en esa ley de salud pública un órgano asesor disciplinar que estudie la incidencia de enfermedades

así como las medidas y políticas a adoptar bueno no sé lo que regulará en su momento la ley

en relación con este órgano pero este órgano ya lo tenemos ya lo tenemos constituido luego podrá ser mejorado y perfeccionado después de la aprobación de la ley de salud pública

hemos propuesto y se ha aceptado que hasta la aprobación de la referida ley el papel del consejo asesor de enfermedades

se regirá por las órdenes por las normas que lo rigen

en lo relativo al consejo asesor es necesario en ese sentido pensamos nosotros desempolvar su estado y hacer que los expertos tengan un papel fundamental

en la situación actual pensamos que es necesario que haya ese esfuerzo que entró medida en un paréntesis que desde algún punto de vista fue un tanto inexplicable pero bueno están ahí las normas que regulan y yo

del funcionamiento del consejo asesor en el marco de las normas que lo regulan yo creo que tiene mucho que hacer puede hacerlo en esa función además que la orden establecía

consejo asesor para el asesoramiento técnico y la información

sienta mejor o es más oportuno en ese sentido que esto para lo que

y la pandemia y las necesidades de asesoramiento técnico y desde luego pues todo lo demás en relación con seguir asesorando sobre las medidas oportunas

asegurar el control la vigilancia etcétera etcétera yo creo que ese es el elemento fundamental

un esfuerzo presupuestario de reforzamiento de las partidas y

consejos que tienen una virtualidad que es la de asesorar técnicamente científicamente a los políticos a la hora de tomar las decisiones yo creo que en ese sentido

para finalizar el foro de la salud pública y de vacunas de junio del veinte que decía que la pandemia provocada por la covid diecinueve ha puesto en jaque a un sistema sanitario que ya tenía otros problemas que ya tenía otras necesidades y que tenía importantes desafíos globales no por ello se hace más necesario que nunca que los gobiernos tanto nacionales como autonómicos incrementen la inversión en salud pública con el objetivo de poner en marcha planes estratégicos que

y promover la salud esa era la intención de nuestra moción nos alegramos del acuerdo alcanzado

tellería y al señor rico su disposición y en ese sentido pues yo creo que

egun on berriro sobre la necesidad de reforzar la salud pública

con el señor barrio y además esto supone necesidad de reforzarla presupuestariamente nosotros estamos de acuerdo porque creemos

y que esto además tiene unas consecuencias concretas de otras precisamente que la atención primaria tenga que asumir trabajo de una salud pública muy limitada

nosotros pensamos y así venimos insistiendo también en las últimas semanas que es más necesario que nunca reforzar la atención primaria y reforzarla

muy importante porque queremos insistir en esa idea

que de alguna manera evite o ha evitado que nosotros podamos haber estado incluidos en ese acuerdo al que ustedes han llegado

no nos necesitan para sacar la iniciativa sino tal vez mi grupo podía haber hecho un mayor esfuerzo nosotros incluíamos garantizar en los próximos presupuestos

y una cuestión muy importante adquirir un compromiso presupuestario de no menos del veinticinco por ciento del total de cada osi a la atención primaria para disminuir listas de espera en los centros de salud a un máximo de cuarenta y ocho horas mejorar

además venimos insistiendo también lo planteábamos en la anterior legislatura es cierto que la cuestión no es solo cuánto pero es importante saber cuánto y aquí nosotros pues lo planteamos

respecto a la riqueza pero es cierto además

que junto al cuánto pues es importante hablar del cómo ya que no destinamos más recursos

que los va a haber y más inversión siendo necesarios pues no son suficientes hace falta en nuestra opinión descentralizar procesos de organización y gestión hacia los centros de salud para ello pues la atención primaria debe tener un mayor peso también dentro del propio presupuesto

pues es posible que perdamos tiempo dinero y eficacia en los trabajos puestos en marcha para evitar contagios para evitar ingresos hospitalarios en esta situación de pandemia y evitar al final ingresos en uvi y finalmente además muertes por coronavirus y por otras patologías

que en la enmienda una transacción que han firmado hay avances no sé si

o la he traído y se habla de refuerzo y lo reconocemos

pero es verdad que a nosotros nos hubiera gustado poder concretar

presupuestaria sobre el tema del consejo asesor

a la consejera ayer mismo se lo expresamos nosotros

este consejo ya sé que el gobierno no comparte esta opinión pero desde luego nosotros en este momento es la opinión que tenemos en base a lo que nos trasladan los profesionales

nuestro grupo parlamentario un consejo técnico no político con una amplia visión de las enfermedades infecciosas epidemiólogos salubristas infectólogos microbiólogos

un consejo que tuvo su primera reunión sobre covid a finales de enero que fue el primero en pedir epi y pes que instó a la atención no

un consejo que pensamos que de alguna manera ha sido desoído y también en cierto modo

comité director entendemos el papel político y el papel técnico que tienen que tener unos y otros elementos pero pensamos que de alguna manera

más político en su día nekane murga sustituyó al consejo asesor de enfermedades infecciosas

de los periodistas les decía literalmente les puedo decir que en el último mes han estado reunidos estamos hablando creo que de abril mayo y realizan sus funciones con total normalidad son las personas en quien tenemos la máxima

parecido a lo que nos están diciendo ustedes ahora a lo que nos dijo el señor berraondo ayer mismo pero nosotros

nos trasladan esa preocupación aseguran que algunas de las recomendaciones de estos expertos

plantearon entre otras medidas desoídas mayor control en las residencias de mayores murga decidió crear el denominado comité de dirección formado por el viceconsejero iñaki berraondo y otros gestores de su confianza y pensamos que eso ha dejado en un

en pandemias en estos momentos el departamento de salud tiene en este sentido un equipo para seguimiento de la pandemia en nuestra opinión

y microbiología me gustaría señalar además que el nuevo órgano bautizado como comisión técnica

por seis hombres ninguna mujer nosotros pensamos

que en euskadi hay mujeres expertas en esta materia no entendemos que este haya sido el resultado

yo comparto algo que ha dicho el señor barrio bueno esperaremos a la ley veremos

tiene ese órgano pero en estos momentos pensamos que este consejo ya existe pensamos que este consejo debe tener un papel más importante nosotros trasladamos la preocupación

de que no se les está teniendo en cuenta suficientemente y esto es lo que planteamos nosotros planteamos que se les debe dar un papel relevante a este consejo

nuestra enmienda y nos vamos a abstener al acuerdo al que han llegado sobre todo por

la cuestión presupuestaria que en estos momentos nos parece

muchas gracias señora presidenta efectivamente señor barrio la

de las líneas estratégicas a seguir por el departamento

estratégico que yo creo que en gran parte ha facilitado también esas incorporaciones al acuerdo en la transaccional a la que hemos podido llegar

absolutamente de acuerdo no solamente por un afán de mejora continua sino porque es evidente que la pandemia de la covid diecinueve nos ha puesto nuevas necesidades encima de la mesa

es evidente que la configuración ordinaria de los diferentes sistemas sanitarios no estaba pensada en la clave de hacer frente a una pandemia y esto ha hecho que se hagan esfuerzos

profesionales e incluso por los ciudadanos para adoptar medidas y para adaptarnos

de este tiempo cuando presentó las líneas estratégicas la sailburu

hablábamos de dos ámbitos algo diferenciados que en realidad también son complementarios uno es las inmediateces

y luego es el reforzamiento general del sistema vasco de salud que también tiene que aprender de las nuevas necesidades de este tipo de pandemias por lo que pueda venir en un futuro y la

explicó las numerosas actuaciones en ese ámbito de lo inmediato

realidad que vivimos desde marzo la constitución de comités técnicos el establecimiento de protocolos de diagnóstico la elaboración de los planes de contingencia planes de adquisición de equipos respiradores torres de anestesia

plan de recursos humanos para reforzar las plantillas de las uci el desarrollo de consultas telefónicas en atención primaria no voy a detenerme porque está

a la hora de abordar el contenido en resumen

a afrontar la situación epidemiológica en la que nos encontramos

servicios con un objetivo claro que es garantizar la asistencia de la forma más segura posible yo también en esa comparecencia lo dije y ayer mismo lo repetí

de salud yo creo que hay que ser claros con la ciudadanía y decir evidentemente que la situación epidemiológica va a seguir condicionando la estrategia a desarrollar en los diferentes dispositivos asistenciales y que esto se aplica tanto a hospitalizaciones como a uci como a emergencias como a atención primaria

la covid diecinueve nos está obligando a reorganizar toda la asistencia sanitaria

para seguir garantizando la seguridad tanto de pacientes como de profesionales y estas situaciones lo decía la propia sailburu en su intervención

para la ciudadanía pero responden a parámetros de seguridad

para abordar esta pandemia y su mantenimiento o modificación en cualquier caso tendrán que venir de la mano del análisis de la evolución de la propia

sea lo único que se tiene que hacer no lo decía la propia sailburu y hay unos compromisos de mejora y aquí entramos dentro de esos ámbitos

de la gestión de esta pandemia estamos de acuerdo en que hay que reforzar la atención primaria es uno de los objetivos recogidos dentro del marco estratégico el incremento de la plantilla tanto de personal facultativo como de enfermería ese reforzamiento de la atención primaria también tiene que venir en ahondar en la integración asistencial en la integración de la salud pública en el ámbito de la atención primaria para integrar los

osi creemos se recoge también que hay que mejorar la accesibilidad al sistema porque también hay que dar una respuesta clara

de la pandemia para pacientes no covid hay que seguir reforzando la red de vigilancia nos informaba la saiburu del constante incremento del número de rastreadores ya hemos sobrepasado los seiscientos

con un diálogo social permanente como la sailburu ha

tendida y con carácter general en lo que

tanto en la presentación como ya le adelantó en la respuesta a su interpelación creemos que es necesario

de salud pública yo creo que la base tiene que ser algo tan simple pero por ello tan importante como concebir la salud como un derecho fundamental y además es una oportunidad para reforzar a través de esta ley los sistemas

de la salud comunitaria se recoge también en el acuerdo de gobierno la creación de un comité permanente para asuntos epidemiológicos y además con

y con los organismos europeos creados en ese ámbito el plan de salud dos mil veintiuno dos mil veintiocho que

a las nuevas amenazas o el objetivo más genérico y muy importante de consolidar la plantilla las condiciones laborales y esa ope entre dos mil veinte y dos mil veinticuatro de cuatro mil plazas

y señor barrio tiene usted razón estos compromisos necesitan efectivamente de luego estar recogidos en unos presupuestos y yo creo que

a una enmienda transaccional porque es evidente que todos estos compromisos tienen que tener luego una transacción a los presupuestos si no difícilmente podríamos realizar las ope difícilmente se podrían realizar las revisiones de infraestructura o las ampliaciones que se estimaran

yo agradezco la mano tendida a llegar a este acuerdo y creo que

resulta que no al final de su intervención

ese comité asesor famoso y nos lo puso en la moción así en principio visto parecía una especie de manzanas traigo

y en la moción ni la una ni la otra porque hombre algo se aproxima pero cuando habla del reforzamiento presupuestario que está muy bien habla de todo el presupuesto no solo de las inversiones cuando usted en aquella interpelación que todo el presupuesto era de gasto corriente luego se entendía que iba buscando un incremento en otras partidas y cuando habla de consejos asesores no habla de la compra de vacunas salvo que yo me haya perdido en el marasmo de conceptos que se trataron entre interpelación y moción sin más

pero es que reconozco que me resultaba intelectualmente imprescindible comentar que en gran parte la moción nada tenía que ver con la interpelación y a pesar de

es la primera moción que llevo esta legislatura y pum bingo

pero no podía dejar de comentar cómo ha llegado aquí esta moción y vayamos por partes ya en la moción porque realmente tiene dos partes que nada tienen que ver la una con la otra salvo que ambas interpelan a un mismo departamento

pero en conceptos en principio poco tienen que ver en la primera

ahora le instamos al departamento de salud a que refuerce presupuestariamente el programa de salud pública en proyecto de presupuestos veinte veintiuno

resulta que en el programa de gobierno ya se habla de la intención de mejorar la integración

en ese mismo programa de apertura de nuevas infraestructuras y de remodelación y reforma de aquellos centros de atención primaria que lo necesiten

los programas y la cantidad que se les asigna se aprueban aquí en debate parlamentario por eso nosotros le solicitamos independientemente de la cantidad que se asigne que incorpore ya

en el programa del gobierno vasco que es lo que entendemos que es lo lógico porque no vamos a entrar a discutir si la formación en epidemiología es poca o mucha siendo de quince mil euros porque yo desde luego no tengo ni idea

o saben ustedes como se citó en la interpelación si cinco mil euros para el tipado de enfermedades emergentes es mucho un poco

pero seguramente la mayoría del resto de años haya sido suficiente incluso haya sobrado

no obstante habiendo aceptado transaccionar con la enmienda presentada por nosotros nos ha parecido correcto añadir la de reforzar los programas referidos al control y vigilancia epidemiológica que ya la entendíamos incluida pero

en cualquier caso agradecemos de verdad el esfuerzo de acordar porque si un grupo quiere ya ven que nosotros tenemos disposición a ello si ni nos llama

no vamos a ponernos de rodillas a intentar pactar con los demás

pero creemos que es bueno para el país para el parlamento y para la tranquilidad social creemos que lo lógico es que el gobierno

y lo proyecte en los presupuestos equilibradamente a lo comprometido lo que parece lógico

entre otras cosas es coherente con lo comprometido lo que definitivamente ocurra lo será además en esta sede pues en nuestras manos en las de esta cámara está dotar

definitivamente en el presupuesto de un modo suficiente a la salud pública y al resto de partidas del presupuesto

dispuestos a acordar respecto al segundo asunto tratado en su moción que no es otro que intentar pedir la definición clara del consejo asesor de enfermedades infecciosas emergentes

ya por orden del consejero de salud en mayo del dos mil dieciséis al hilo de la aparición del virus zika de hecho en el artículo uno se dice que se crea para analizar el virus zika y sus misiones y composición están descritas

y luego hay un decreto previo del dos mil cinco que dice cómo se funcionan todos los consejos asesores del departamento de salud ese consejo este sigue estando activo y emite los informes que cree oportunos por otro lado

este gobierno se compromete a crear un comité permanente para asuntos epidemiológicos el uno el otro

deberán definir o redefinir en su momento sus contenidos con más precisión

pues parece además que es el marco jurídico para darle una conformación estable y consistente que no lleve a malentendidos o confusionismos interesados

luego cuando llegue el proyecto de ley de salud pública a esta sede aquí la debatiremos todos los grupos para que de aquí salga esa nueva ley que contendrá definición objetivos contenidos de todos los comités que los grupos parlamentarios entendamos deban existir para la mejor gestión de la salud pública también hemos aceptado una transacción en ese punto y también lo agradezco

asesor existente siga funcionando según la orden que lo creó que es lo lógico no vamos a crear ahora una nueva orden porque a alguien se le ha ocurrido a la espera de la ley de salud pública porque es lo normal lo que hay que

pues nadie ha puesto en cuestión su trabajo y cuando la ley llegue a esta sede también pactaremos

como curiosidad tres expertos del comité asesor están en el comité técnico de elhabi y

quizás debería de si son sus asesores técnicos los que le cuentan pues por qué no amplía un poquito el círculo de sus relaciones porque a lo mejor obtiene otras informaciones

talde guztiekin eztabaidatzea con esto

pero creo ya que me queda tiempo que merece la pena solo como otro ejercicio intelectual que ya ven que vengo con esas ganas

ha citado reiteradas veces que tales afirmaciones la de reforzar salud pública

que fueron los temas que se trataron vienen de anteriores debates de expertos que han llegado a tales conclusiones pues bien y entendiendo que los expertos son necesarios en todas las áreas de conocimiento

pues algunas veces yo me he encontrado con afirmaciones

en determinados foros que no eran tan sorprendentes después de que observabas o entendías a algunos promotores de los mismos lo digo para que estén todos sobre aviso al forismo exacerbado al que hemos llegado muy próximo al forofismo

aunque me preocupa que algunos lo dicen con la boca torcida como añorantes de tener lo que no poseen lo que sí les digo es que aparte de que también hay políticos que tienen conocimientos científicos y científicos que políticos que tienen conocimientos científicos y científicos que tienen poder

lo normal es que el conocimiento se ponga al servicio del poder democrático para que este pueda acertar en sus decisiones cuando las tienen que ser sobre un sustrato de conocimiento y que el poder es porque ha pasado un filtro democrático de elección como es el caso como colofón

en un gran foro y después de unas sesudas y largas y costosas reuniones

de modo público y evitando problemas de suministro y abastecimiento

buenos días a todos en primer lugar quiero manifestar mi sorpresa por el título de la moción que nada tiene que ver con el contenido de la misma que nada tiene que ver con las vacunas contra el covid diecinueve aunque el tema que plantean no carezca de interés

decidió dejar en segundo plano al consejo asesor de enfermedades infecciosas emergentes

más político más pegado al ejecutivo más condicionado por las siglas que por la realidad de la pandemia así que hoy que la coalición de gobierno va a volver a pasar su rodillo

decidida por una gestión política de una crisis sanitaria también los criterios científicos y los informes técnicos

pueden aprovechar este momento para ser sinceros con la ciudadanía a la que representan y contarnos cómo y por qué toman determinadas decisiones explicarnos sus planes

cómo van a evitar el colapso total el crac económico y el cierre de miles de empresas

a atribuir decisiones a expertos que no conocemos y volverán a tapar con una cortina de humo ese comité técnico de la covid diecinueve coordinado por el señor

en compromiso con la verdad y en imparcialidad y junto a él un epidemiólogo y un notable elenco de cargos de confianza de hombres con poco perfil técnico se pueden imaginar cómo nos sentimos tantos miles de vascos sabiendo que estamos en estas y otras manos tan poco capacitadas tan poco comprometidas con el bien común y tan dependientes del poder político y ya sobre la

pero qué menos que comentar cuánto más y de dónde estiman que debería salir este dinero sobre el consejo de enfermedades infecciosas había que clarificar sus funciones ahora que el covid diecinueve campa a sus anchas por nuestras calles su composición

sabiendo que necesitamos un comité de expertos más potente de expertos en sanidad en gestión de crisis en coordinación de recursos en atención a colectivos en riesgo en comunicación en el abordaje de crisis económica en legalidad vigente

y como prueba tenemos la enmienda de los partidos de gobierno yo de verdad que quisiera creerles pero no puedo

vamos a reforzar la atención primaria tantas veces se ha incumplido así que no no les creo

proponen ahora crear un nuevo órgano asesor sobre enfermedades infecciosas primero lo descabezan después lo condenan al olvido y ahora proponen volver a crearlo
supongo que es su particular modo de responsabilidad política muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

criticar un poco alguna actitud seguramente parlamentaria en relación con la interpelación en relación con la moción a mí

el análisis me hace actuar cada vez mejor o no pero yo intento que me analicen

presento la interpelación y cómo presento la moción porque

en esta moción señor tellería es el querer llegar a un acuerdo y yo presenté una moción no para el desacuerdo

los grupos parlamentarios los políticos presentan cosas para el desacuerdo o para la confrontación yo he querido presentar una moción para llegar a un acuerdo

compromiso de reforzamiento de algunas cuestiones que hay que reforzar y

que el parlamento está trabajando en eso

programas de salud pública que lo hace en consonancia con expertos efectivamente que hay veces que

muy generales pero son expertos y algunos de ellos que conocen muy bien nuestro sistema sanitario

vuelvo a decir hay algunos que son muy próximos a nosotros y que hablan de estas cuestiones

la sociedad también percibe esas necesidades yo entiendo y vuelvo a decir que el consejo

las normas que dirigen el consejo asesor actualmente son correctas

y eso es lo que queremos que se apliquen sus funciones su composición la que determine desde luego el gobierno en relación con los mejores y que eso se lleve a cabo luego efectivamente el debate parlamentario o la discusión sobre la ley de salud pública yo creo que será muy interesante también ahí será

de contribuir hemos adquirido mucha experiencia en algunas cuestiones así que yo creo que ese es el elemento fundamental el hecho de que yo haya presentado una moción efectivamente mire de las vacunaciones era un poco en el marco también de aquellas cuestiones de salud pública que van unidas

en el reforzamiento de los programas de salud pública va a ir también implícito el reforzamiento de la adquisición o de la política estratégica en relación con las vacunas no yo creo que eso es así y lo considero integrado

yo comparto las cuestiones que ha tratado la señora ubera en este momento yo creo que es importante también en ese marco de debate general el tema de los perfiles profesionales del empoderamiento de la población de la participación

y hay que trabajar efectivamente hasta la ley hay que trabajar con lo que hay y tenemos cosas buenas o sea que vamos a ponerlas
en práctica o sea que estoy de acuerdo con eso muchas gracias eskerrik asko barrio jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria

a la señora ubera al grupo eh bildu pues nos trasladaban ayer que en caso de votación de nuestra enmienda la hubieran

desde el escaño si me lo permite pues yo

agradecer como he hecho en la primera intervención la disponibilidad para llegar a acuerdo sinceramente señora ubera cuando nos dice que usted estaba descolocada yo puedo entender como se ha hecho alguna mención a que igual ese descoloque viniera

pero no en la enmienda transaccional a la que hemos llegado o en el debate porque se incluye prácticamente de forma íntegra lo que el señor barrio nos planteaba por lo tanto los elementos

que en el debate de la interpelación se hablaron de algunas otras cosas que no han sido incluidas en la propia moción y yo hay una cosa que no me resisto a la representante de vox

que viene con un papel y lo va a leer digamos lo que digamos tanto en las primeras intervenciones como en la réplica nos dice que vamos a aplicar el rodillo cuando hay una enmienda transaccional

del papel imagino pero luego además viene aquí en el

a plantear preguntas insidiosas siempre sin ninguna respuesta

siempre sin ninguna respuesta y hoy aquí nos ha dicho que no va a creer a este gobierno

y lo ha mezclado con temas del ámbito laboral de las ayudas a autónomos etcétera etcétera

yo ante este tipo de cosas lo único que puedo hacer es ponerle el espejo señora martínez

votaron a favor con esa medida de protección que se hizo para la ciudadanía qué dijeron ustedes del ingreso mínimo vital que protege

dijeron que era la paguita que era una broma qué pensaban ustedes y qué piensan ahora

interprofesional yo señora martínez lo que le pido es coherencia y que si usted va a venir aquí a trasladar da igual lo que debatamos

de posiciones que no tienen nada de fondo al menos cuando vea aquí cuáles son las posiciones de los demás pues rehaga un poquito el discurso nada más y muchas gracias

no intentaba ni reprocharle ni cómo le voy a pedir yo a usted que mejore su actividad parlamentaria si lleva aquí el triple de trienios que yo quiero decir que en cualquier caso si le ha sentado mal pues mis disculpas pero

análisis intelectual de cómo una interpelación se transforma en moción en términos generales lo que ha venido a ser la enmienda transaccional y lo que venía a pedir es algo que tarde o temprano va a venir a este parlamento

a los proyectos que van a venir aquí los presupuestos las leyes etcétera etcétera y mire señor hernández yo mire

en las comunidades autónomas en las que cogobiernan que las hay les escucharé mucho más atentamente porque la lógica es que alguien pida

se comprometa a hacer y dicho esto que vuelve a enfadarse conmigo para que se tranquilice

unión soviética y ya con eso ha dicho usted que se queda tranquilo miren

dos mil diecinueve el gasto por habitante en sanidad fue de mil setecientos treinta euros en dos mil veinte

el presupuesto de sanidad del gobierno vasco es de más del treinta y tres por ciento del presupuesto total españa en dos mil dieciocho y según el ministerio estaba en el seis coma tres por ciento de gasto de sanidad pública frente al pib y gasta mil seiscientos trece euros por persona

según eustat en dos mil ocho el gasto en euskadi era del cinco por ciento del pib y en dos mil dieciséis de seis coma uno del pib no ya

mi pregunta es qué prefiere tener más tanto por ciento sobre el pib o más gasto por persona

eso sí cada décima que subamos supone un esfuerzo presupuestario gigantesco gigantesco también podemos hacer bajar mucho el pib y entonces tendríamos un porcentaje altísimo

hecha trizas del consejo asesor de enfermedades infecciosas ya les he dicho que está organizado funcionando perfectamente

lo hace emite informes cuando quiere porque eso lo dice la orden o cuando se le piden que se la han pedido y no hace tanto tiempo de hecho muchos protocolos que hoy están funcionando los ha emitido eso luego se creó un comité de gestión no hay que equivocarse

más allá de los estrechos que están teniendo amplíen

y verán cómo tienen unas informaciones mucho más ricas y más creativas que las que están haciendo por cierto esta enmienda que ha presentado es muy casi clavadita por lo menos en el cincuenta por ciento a una a una moción presentada y todavía no sustanciada con lo que le he dicho hoy dé por que el cincuenta por ciento ya lo tengo ya hecho para ahorrarme

ya está esperando lo que le voy a decir ya sé que la oposición se siente muy cómoda pidiendo porque independientemente de que piensen que ese es su trabajo es relativamente sencillo

independientemente de que parte de lo que piden en su enmienda en las suya señor hernández es también

pero bueno en cambio me gustaría sí me gustaría una cosa que cada vez que presenten una pnl ya más concreta de las de pedir que son muchas

la cuantificación en euros de las mismas básicamente para que yo mi grupo parlamentario y la ciudadanía en general sepan de qué estamos hablando es como cuando mis hijos que de vez en cuando vienen a comer a mi casa para saludarme

por qué no cambias las persianas no sé por qué lo hacen si para que yo sea más feliz o para cuando ellos hereden la casa la tengan en mejores condiciones pero yo siempre les digo mira me traes la factura y ya veremos de qué estamos hablando

la sanidad en euskadi es un ejemplo de servicio público magnífico y por cierto magníficamente valorado es un servicio que no sufre recortes y que no los va a sufrir

por el trabajo del personal sanitario pero también porque hay una organización y gestión detrás que ha mantenido el sistema en pie muchas gracias eskerrik asko

en primer lugar agradecerle que se dirija a vox ya están aprendiendo por lo que veo algo de lo que es la democracia sabe usted

de la que han presentado ustedes con sus diferentes parches las medidas de vox buscan ayudar a la sociedad lo suyo es todo fantasía
ni tan siquiera el banco de españa se creen vuestros propios presupuestos muchas gracias eskerrik asko

sailburuak legebiltzarkideak egun on bueno antes de comenzar quisiera agradecer la presencia del vicelehendakari primero y consejero de seguridad josu erkoreka así va a tener la oportunidad de asistir al debate de una aportación constructiva real como aportaciones constructivas reales se debatieron el jueves pasado y el anterior y el anterior

para preparar los centros residenciales para personas mayores ante una segunda ola de la covid apuntábamos la siguiente paradoja

aunque discrepáramos en cuánto existía un más que amplio consenso en torno a la necesidad de reforzar los sistemas sanitario

acaso no se ha visto no se ve seriamente golpeado por la crisis tal vez

el problema sea que no han alcanzado aún a comprender la importancia de la protección y del cuidado de la ciudadanía hace unos días

sino de quien la necesita a lo que yo añadiría que la prosa también así que me van a permitir

definía el cuidado como una trama oculta una trama que nos está sosteniendo en la salud y en la enfermedad en la vida cotidiana

fugaces muchas veces automáticos sin esos actos no serían posibles si el dormitorio no hubiera sido limpiado la médica no podría entrar en él si no hubieran llamado a aquella persona desde los servicios sociales no se hubiera conocido su situación de soledad no deseada si esa comida no hubiera sido preparada con cariño

si nadie me hubiera ayudado a levantarme a estas horas seguiría en la cama cuánta tensión está soportando esa trama esa trama oculta se pregunta fantova lo cierto es y a mí me gusta utilizar los datos pero los datos

no nos dicen cómo se desploman de cansancio las cuidadoras cuándo lloran de impotencia si enferman o incluso si mueren damos por sentado que nos seguirán cuidando

como nos recordaba la consejera de igualdad justicia y políticas sociales la señora artolazabal hace poco más de una semana no hay motivo por el que preocuparse siempre habrá una mujer

que se haga cargo de esta atención un apoyo que el gobierno vasco quiere preservar una situación que consideran socialmente sostenible

porque nosotras consejera también nos hacemos preguntas

al trabajo doméstico no remunerado y al cuidado merecería la pena que siete de cada diez personas cuidadoras de personas mayores dejaran de ser mujeres merecería la pena que dos de cada diez cuidadoras tuvieran apoyo del resto de su familia

dedicadas al cuidado merecería la pena que una de cada cuatro cuidadoras de personas dependientes no hubiera tenido que renunciar por completo a su vida social

ese es nuestro modelo eta horregatik gaur

con estas dos monedas debe hacerse frente a quien ha visto cómo el centro de día que atendía a su familiar

a quien vivía en la calle y ahora solo ahora es tratado como un problema a

necesita que se provea de relaciones y así

con dos monedas incluso a judas los sumos sacerdotes le dieron treinta monedas ahora que hablamos de fondos

y agenda dos mil treinta un capítulo que nos muestra que el departamento de igualdad justicia y políticas sociales tiene un problema de actitud

solo debe ejercer meras labores de mediación es evidente su extremada falta de diligencia

gizarte larrialdietarako laguntzak alegia lo más gracioso de todo esto es que a día de hoy la consejera todavía

urgencia mostrada por el ministerio tanto para el reparto como para recibir la justificación del fondo no sé consejera no sé déjeme pensar

qué razones de urgencia puede haber para reforzar la protección y el cuidado de las personas ha entendido el sarcasmo

los últimos años noventa millónes de euros noventa millónes de euros cuyo destino era el despliegue del sistema vasco de servicios sociales

aunque seamos justos el departamento de igualdad justicia y políticas sociales no es el único que tiene una relación digamos un tanto azarosa con los fondos finalistas procedente del fondo covid diecinueve aprobado por el gobierno del reino de españa la comunidad autónoma del país vasco ha visto reconocida al menos reconocida no sabemos si todavía abonada financiación procedente

millónes de euros para el primer tramo y ochenta y siete coma veintitrés para el tercer tramo aunque no se encuentran condicionados la finalidad del primer tramo es afrontar el gasto en salud

ninguno de los dos departamentos ha visto aumentada en la misma media a día de hoy su dotación presupuestaria inicial finalizo mi intervención finalizo mi intervención haciéndoos partícipe de la enorme preocupación que sentimos muchas mujeres y hombres de euskal herria bildu todo lo descrito hasta ahora

se ha abandonado el marco de la ley de servicios sociales y se han roto unilateralmente los consensos alcanzados en diciembre de dos mil catorce para desplegar el sistema como por cierto antes se abandonaron

por desgracia nunca estuvimos tan lejos como ahora de alcanzar un sistema vasco de servicios sociales de responsabilidad pública universal

y nunca estuvimos tan lejos y nunca fue tan necesario eskerrik asko eskerrik asko

marcó un hito en nuestra legislación y en lo que se refiere a los servicios sociales a configurar como derecho

a las distintas prestaciones y servicios que configuran el sistema vasco de servicios sociales sin embargo podemos decir que doce años después

que tanto su desarrollo como su capacidad de respuesta ante muchas de las situaciones a las que tenía que

y por otra parte el desarrollo de esta ley ha sido muy lento y muchas de las previsiones contenidas en la misma a día de hoy no han sido todavía

hora de aprobar los respectivos reglamentos también se han aprobado

largos en el seno del propio gobierno vasco en ese sentido

que entendemos que ha habido una falta de liderazgo por parte del gobierno vasco a la hora de impulsar el desarrollo reglamentario de esta ley

diferentes prestaciones y servicios contemplados en la ley hoy eh bildu nos trae una iniciativa concreta en relación al fondo interinstitucional

sociales sin duda desde el grupo la coalición partido popular ciudadanos entendemos que en el escenario actual de incidencia

de forma imperiosa y que tiene que ser una prioridad absoluta de este gobierno proceder al desarrollo reglamentario de la ley de servicios sociales en aquellos

y desde luego reforzar aquellos servicios que sean necesarios

para dar respuesta sobre todo a los colectivos y a las personas más vulnerables

sociales para reforzar necesidades de los servicios sociales municipales nosotros aun coincidiendo

con esta afirmación y

con este mandato específico al gobierno vasco en relación a la ampliación de este fondo interinstitucional sin entrar a matizar luego algunas cuestiones para lo que ellos obviamente consideran que hay que ampliar este fondo

de los servicios sociales de los servicios y prestaciones que configuran el sistema vasco de servicios sociales nosotros creemos que es necesario ir una cuestión previa que lo hemos además planteado no solo en este parlamento

juntas generales de los distintos territorios históricos que es instar ya al gobierno vasco a la revisión de la ley de aportaciones para garantizar

a las instituciones que legalmente tienen atribuidas las competencias

de prestaciones en la cartera de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales del año dos mil quince por lo tanto revisión la modificación de la ley de aportaciones consideramos que es una cuestión previa que es absolutamente necesario cuando hablamos de dotar de más recursos a las instituciones forales a las instituciones municipales para que puedan ejercer las competencias que legalmente tienen atribuidas en

sociales sí que es cierto que sí consideramos oportuno que mientras dicha revisión de la ley de aportaciones y de los coeficientes de reparto de recursos entre el gobierno vasco y las diputaciones forales que mientras este hecho no se produzca

venimos reivindicando desde hace mucho tiempo consideramos que sería también

ampliar la financiación o el fondo interinstitucional para la financiación del conjunto de prestaciones y servicios que configuran el sistema vasco de servicios sociales y otra de las cuestiones que hemos planteado en nuestra enmienda de totalidad es algo que también

ha venido también reclamando el grupo popular al gobierno vasco y que en este caso lo hemos contemplado el grupo popular ciudadanos en nuestra enmienda como decía de totalidad que es que el gobierno vasco asuma ya de una vez por todas

porque como también sabemos hay centros residenciales servicios específicos cuya competencia de gestión corresponde a las diputaciones forales

que específicamente en algunos territorios aunque haya convenios que realmente señalan cómo se tienen que abonar esos gastos en virtud de esos convenios y el caso muy llamativo es del territorio histórico de álava no se

y pedimos al gobierno vasco que ya de una vez por todas asuma el gasto sanitario en que incurren las instituciones forales a la hora de prestar los servicios sociales que tienen encomendados

que hemos presentado consideramos que es más exacta que no se circunscribe simplemente al fondo

a la revisión de la ley de aportaciones y también a que el gobierno vasco asuma este gasto

ellas como decía es muy evidente el caso de la diputación

de que mientras no se modifique la ley de aportaciones se pueda ampliar dicho fondo interinstitucional para que se pueda dotar de mayores recursos a las instituciones competentes en cuanto a las terminas presentadas

en principio creemos que la enmienda del partido nacionalista vasco y el partido socialista plantea algunas cuestiones que pueden estar bien pero sí nos hubiera gustado también pues un mayor

a la financiación de las competencias que tienen las instituciones forales y municipales a la hora de prestar los servicios y prestaciones que tienen encomendadas en función del decreto de cartera

de varias cuestiones que vienen a señalar que en esta materia y vienen a corroborar mejor dicho que en esta materia hay muchas asignaturas pendientes porque

hablan de elaborar el segundo plan estratégico de servicios sociales hacen referencia también a consolidar el fondo interinstitucional sí que es cierto que no hablan de ampliar como hace el grupo proponente y como nosotros hacemos en nuestra enmienda lo cual a nosotros nos hubiera parecido mucho más adecuado a las circunstancias actuales

evaluar y culminar la cartera de prestaciones del sistema vasco de servicios sociales por lo tanto creo que también en las cuestiones aquí recogidas en esta enmienda queda también

pues obviamente no ha sido lo diligente que tenía que haber sido y que quedan muchas cuestiones pendientes que espero que esta legislatura se aborden

a las necesidades y problemas que tenemos en el ámbito de los servicios sociales y que aun todavía pueden persistir para dar una atención de calidad

sí gracias presidenta tal como señala el primer plan estratégico de servicios sociales de la comunidad autónoma

el fondo interinstitucional constituye una fórmula de colaboración financiera relativa al reajuste financiero entre administraciones públicas vascas

financiera para la provisión del catálogo de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales en los

dicha fórmula se nutre de coeficientes verticales de distribución entre los territorios

horizontales siendo posteriormente cada territorio el que decide cómo se distribuye

el diseño del fondo más bien tiende a insertarse en el modelo de distribución de recursos entre los distintos niveles de las

y este fondo va orientado a servicios poco desarrollados y nuevos los socialistas vascos creemos que el principal instrumento para informar sobre el despliegue del sistema vasco de servicios sociales

y servicios del catálogo a las que pretende contribuir el fondo es la evaluación

y precisamente la evaluación del primer plan estratégico de servicios sociales de la comunidad autónoma vasca está efectuándose en estos momentos

y dentro del mismo se recogerán recomendaciones importantes a tener en cuenta

la elaboración del segundo plan estratégico de servicios sociales que una vez finalizado deberá de pasar por el órgano interinstitucional de servicios sociales antes de presentarse definitivamente y que podría estar ultimado para el primer semestre del dos mil veintiuno

se propone que se solicite al consejo vasco de finanzas públicas

de las actuaciones del desarrollo del sistema vasco de servicios sociales

la ampliación del objetivo del fondo para cubrir las necesidades derivadas del covid diecinueve y también se solicita lo mismo

por el grupo popular ciudadanos en la enmienda a la totalidad del grupo nacionalista vasco y el grupo socialista se recogen una serie de solicitudes

insta al gobierno vasco y al resto de instituciones competentes en la materia a que se proceda a elaborar este segundo plan

a consolidar este fondo interinstitucional de servicios sociales con el objeto de garantizar las prestaciones y servicios contemplados en el decreto de cartera

este decreto a fin de avanzar en la planificación coordinación y desarrollo normativo de los servicios y prestaciones del catálogo así como adoptar un modelo de financiación sostenible consensuado entre las instituciones competentes en la materia

sociales y creo que este es el camino para mi grupo parlamentario la consolidación del fondo de compensación es importante

asumidos dentro del acuerdo de gobierno firmado por el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista todos los puntos que se recogen dentro de la enmienda a la totalidad que hemos presentado están recogidos específicamente ya dentro de ese acuerdo

es cierto que hay que tener en cuenta que hay necesidades extraordinarias que se derivan del covid diecinueve que no se podían prever en ningún caso pero para ello podemos tener dos vías o bien aumentar las cuantías del fondo interinstitucional o bien también

a esas necesidades específicas derivadas del covid diecinueve ya que son

excepcional y esta es la vía que se está pensando introducir dentro de los presupuestos generales de la comunidad autónoma vasca

de este incremento por motivo de covid consideramos que es importante también evaluar este primer plan estratégico de servicios sociales

y adoptar ese modelo de financiación sostenible consensuado entre todas y las diferentes instituciones y es por ello por lo que vamos

por eso tal y como dije el día de la presentación por parte de la señora consejera del programa de legislatura hay que romper una lanza y cuantas sean necesarias por el sistema vasco de servicios sociales y más tras oír determinadas intervenciones un sistema que existe

no exento de aspectos a reformar no exento de mejorar pero que ha demostrado y está demostrando una solidez mayor que la que necesitan los discursos de muchos de los grupos políticos

un sistema que funciona bien razonablemente bien y que funciona de esta manera no solamente por el trabajo y el compromiso de los y las trabajadores

salud versus economía etcétera no admitimos este que tanto se quiere generalizar en ámbitos como la educación

o los servicios sociales de sistema versus trabajadores en el que el mérito y las cosas funcionan solamente por mérito de los trabajadores y el demérito siempre es del sistema

mal que pese sistema y trabajadores van de la mano es un sistema que funciona bien o razonablemente bien incluso en estas circunstancias de presión a nivel comparativo y me van a permitir en este punto que no nos comparemos con españa porque ya sabemos que salimos ganando

no estamos situación equiparable a otros muchos lugares de europa

que es el de la cogobernanza el de la colaboración interinstitucional aitortu beharra dago

eguerdi on guztioi legebiltzarkideok el sistema vasco de servicios sociales junto con el sistema sanitario y el educativo

para que bien vivir vivir bien bien estar y estar bien sean una aspiración posible para todas las personas que vivimos en euskadi

eta gure jarrera azaldu nahi dugu es obvio que la pata municipal es la que más recursos y apoyos necesita es algo que sabemos desde dos mil dieciséis

todo esto al respecto del desarrollo de cartera mientras sigamos sin prestar atención al refuerzo de los servicios municipales de base favoreceremos la desigualdad territorial

a un sistema del que presumimos hoy a este punto del debate hubiera sido importante llegar con un acuerdo porque a tenor de lo leído para todas está claro que la financiación estable de los servicios sociales es una asignatura pendiente hay que pensar cómo queremos financiar los servicios

y además porque sabemos que el plan institucional el de los municipios siempre es el que sale peor parado y por supuesto

y por llevar a cabo las modificaciones pertinentes de la ley de aportaciones para que los porcentajes no estén caducos y atendamos

entonces yo me pregunto dónde está el problema para no llegar a un acuerdo en este sentido

intentar llevarse el gato al agua porque entendemos que el refuerzo es necesario y por eso también creemos que es importante buscar el consenso pero también entendemos que la evaluación del primer plan es absolutamente necesaria evaluar para poder plantear una propuesta de aumento y ampliación del mismo

a la nueva coyuntura a lo que está fallando e incluso introducir cambios cualitativos en el diseño de los servicios municipales halaber ikusi behar dugu

baldintza duinak bermatzen dituen eta abar y contar con las opiniones del tercer sector para esta evaluación que tanto aportan en este ámbito

respecto a la enmienda que plantean los partidos que sustentan al gobierno

en más de una ocasión nos han instado a nosotras a preguntar o a exigir en madrid tal o cual cosa pero aquí estamos hablando sin ningún tipo de pudor pues que ustedes presentan enmiendas con medidas

como partidos del gobierno y lo triste es que la estrategia adoptada para que cualquier labor de impulso del resto de fuerzas parlamentarias en las que proponemos

o para sacudir un poco al departamento de su letargo entonces aparecen este tipo de enmiendas porque ya deberían estar haciendo esto esto que recogen en su enmienda no es un acuerdo a suscribir en esto ya estábamos todas de acuerdo eta bitxia bada ere kanpoan uzten duzue funtsa handitzea

aurreikusita funtsean estaltzea claro que compartimos su enmienda

de abstención pero porque no votarlo es ir en contra de la ley estoy aprendiendo mucho de la hemeroteca de esta cámara

donde se recogen acuerdos y respuestas a solicitudes de información que nos dicen que hay una ausencia de la evaluación intermedia del plan

hace mención a la evaluación de la cartera que entendemos que también incluirá

pero no hay ninguna mención a cuándo se recibirá dicho informe y si está contando con la voz del tercer sector es más se niegan a adelantar cualquier tipo de información al respecto

a principios de dos mil diecinueve elkarrekin podemos presentó una solicitud de información sobre el grado de cumplimiento del plan estratégico era dos mil diecinueve cuando no había covid y contaban con todo un año por delante para llevar a cabo esta tarea y dijeron en su respuesta entre otras cosas en estos momentos era trece febrero de dos mil diecinueve fecha de la respuesta el grupo de trabajo

presentamos otra solicitud de información en julio de dos mil diecinueve y la respuesta llegó en septiembre de dos mil diecinueve

y a regañadientes avanzaban algunos datos cuando se pregunta sobre la información recabada respecto a líneas concretas porque vale que esté o sea que no esté el informe completo pero algo debería haber habido entonces respondían que ponerse a hacer eso era complejo que no era realista

de los gags de ozores de balbuceo técnico en la tele

irailean hori nola zuzendu ez zenutelako y además señalan que el plan estratégico es un instrumento vivo sujeto a modificaciones y que su cumplimiento depende de todos y de todas pues fíjense que tan poco vivo es que no sabemos ni cómo está ni cuál ha sido su desarrollo

como dice el refranero unos por otros y la casa sin barrer en esas andamos

recuerdo por encima la disposición transitoria tercera de la ley de dos mil dieciocho

realizará el correspondiente reajuste financiero entre las administraciones públicas vascas con el fin de garantizar la suficiencia financiera

que en ningún caso podrá suponer una disminución en los niveles de intensidad y cobertura de las prestaciones y servicios

no ha habido disminución alguna en los servicios y prestaciones que teníamos entonces y sobre todo por qué seguimos con un fondo que por tres años cuenta con la misma cantidad

y por qué se hace solo mención en su último punto a la atención a las personas mayores y el resto de servicios que están previstos para poblaciones diana

evaluar y culminar para ellos para la atención a las mujeres a la infancia a las personas sin hogar a las adolescentes que alcanzan los dieciocho años sin poderse emancipar a la población en tránsito a las familias monomarentales

todas de acuerdo en que el nuevo plan estratégico tiene que recoger el desarrollo del decreto de cartera y un nuevo modelo de financiación pero cuánto tiempo vamos a tardar en admitir que lo que tenemos ahora no sirve porque de facto nos encontramos con que los municipios no cuentan con la financiación requerida

aldatu egin delako cuánto tiempo y a costa de cuántas vidas porque el tiempo que pasa es recorte

y estamos en el momento de decidir si vamos a seguir conformándonos con la gestión de la pobreza y la exclusión o apostar por acabar con ella

igual en una posición de inmovilidad si no tenemos

seguiremos dependientes de que quieran demorarse

siete meses tres años si no partimos de las nuevas necesidades detectadas no se puede abordar el despliegue de una cartera que eran los mínimos desde los que partir

al que aspirar entonces si seguimos así seguiremos fracasando muévanse por favor del punto inmóvil en el que están por favor que es urgente eskerrik asko

hablemos en estos cinco minutos del turno de réplica al menos tanto del contenido de los ejes que vertebran la enmienda

como algunos elementos discursivos para rebatir la propuesta que realizaba mi grupo lo cierto es que leía la enmienda y tres elementos bueno leída la enmienda un paréntesis en torno a la enmienda

claro es que cogida la enmienda es un control c control v cortar y pegar pero cortar y pegar del programa ya no del programa de gobierno que está disponible sino el acuerdo para el programa de gobierno pnv pse tanto es así que de hecho en el texto original había un error hay un error que ni siquiera se ha corregido porque hay una repetición de una propuesta

pero bueno dicho lo cual hagamos un siquiera un breve análisis de los tres elementos que vertebran y para eso pues

aiartza de cómo los materiales

y cómo la experiencia que nos dice tanto del plan estratégico como del fondo como de la colaboración interinstitucional comencemos por lo tanto con el plan estratégico

no hay evaluación intermedia del plan estratégico y no la hubo en el segundo semestre del dos mil siete por motivos que desconocemos aun

es muy relevante porque no se limita a hacer el seguimiento de los objetivos del conjunto del sistema sino que era una herramienta que iba a actualizar

de enero de dos mil veinte y eso ha dejado ciego al sistema

que tenían que ser evaluados y revisados en su caso para establecer los objetivos

porque no se hizo la evaluación intermedia por motivos que se desconocen bueno

tiempo habrá de debatirla camina y lleva tres años caminando sin hoja de ruta bueno muy coherente con la ausencia de coordinación

que trasladaba o bueno o en realidad podríamos seguir hablando algo más sobre el plan estratégico

porque el plan estratégico que traen otra vez aquí era la misma evaluación que preveían en el acuerdo de gobierno dos mil dieciséis dos mil veinte que vuelve a estar en el acuerdo dos mil veinte dos mil veinticuatro o sea ustedes me recuerdan en cuanto al desarrollo cumplimiento del plan estratégico de servicios sociales al administrador que todos tenemos en nuestra comunidad de vecinos

que ya iba a resolver en la junta anterior e iban a estar resueltos para esta junta y

y ahí siguen los mismos temas sin resolver pero te vuelve a explicar muy bien por qué no están resueltos y por qué estaban resueltos en la siguiente junta y así

sobre el fondo bueno y en relación al plan estratégico entiende realmente la relación entre el fondo y el plan estratégico

fue fruto no de un cálculo técnico

política de una negociación política que definió los términos de la herramienta y su cuantía es más y le puedo decir que la cuantía se cerró horas antes de la reunión para aprobar el decreto de cartera horas antes en una negociación una negación bilateral

porque cuando la diputación foral de guipúzcoa propuso que ese fondo alcanzara los trescientos millónes de euros los trescientos millónes de euros solo para inversiones

y finalmente y bajo la presión de que no hubiera decreto de cartera se llegó a un acuerdo de mínimos ese es el origen del fondo que es una herramienta política o sea es una herramienta que nació de un acuerdo político

complejo que el sistema siga adelante que las decisiones no se retrasen a mí me sorprende porque no es porque hayan reunido ustedes mucho al órgano institucional de servicios sociales

trimestral trimestral una vez cada tres meses cuántas veces lo reunieron la legislatura anterior hasta febrero que se disolvió la cámara tres veces

tres veces así que por reuniones por trabajo interinstitucional no será que se ha retrasado

y termino termino no es una cuestión del todo o nada que nos decía el señor aiartza

lo de ustedes hoy es nada otra vez como fue nada el jueves pasado y el anterior y el anterior y el anterior y el mejor reconocimiento que pueden hacer al sistema vasco de servicios sociales el mejor reconocimiento es mejorar su financiación

de la diputación foral de álava en ese momento gobernada por el partido popular

de la andadura de esta ley no solo con el inicio sino con el desarrollo de la ley aprobando importantes instrumentos para que pudieran contribuir a ese

de la ley en relación a las prestaciones y servicios contemplados en la misma yo solo quería decirle al señor urrutia

que hombre yo dejaría de lado la autocomplacencia quiero yo creo que es bueno en este momento también

un balance exhaustivo después además de doce años de vigencia de una ley absolutamente esencial que como decía antes configura el acceso a las prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales como un derecho subjetivo bueno pues hacer ese balance ese balance para saber dónde están los déficit dónde todavía hay cosas pendientes y sobre todo para bueno hacer frente a una situación complicada y

y con criterios rigurosos y con un análisis exhaustivo de esa situación poder abordar como decía un escenario complicado con las medidas que sean pertinentes y sobre todo

e implantar aquellos instrumentos que a día de hoy no se han puesto en marcha ustedes mismos han reconocido

del decreto de centros residenciales cuando la pasada legislatura no lo veían un decreto que se aprobó y que se va a revisar al poco tiempo de aprobarse ustedes saben que están pendiente todavía el servicio de inspección

del dos mil ocho que todavía no se ha desarrollado ustedes saben que están pendientes cuestiones como evaluaciones

hacía referencia el portavoz de eh bildu

posiblemente también porque el punto de origen de las tres diputaciones forales

seguimos con diferencias sustanciales en aspectos bastante importantes

un poco de lado y también hacer una modesta autocrítica

andrea euskal sozialistak sánchez andrea bertatik sí desde el escaño

lo recogido dentro de la enmienda a la totalidad son compromisos asumidos dentro del acuerdo del gobierno y que

para finales de este año y que ya se ha iniciado la elaboración de este segundo plan estratégico de servicios sociales que tendremos

que viene y desde luego señor rodriguez nosotros conocemos muy bien la diferencia entre el plan estratégico y el fondo

defendimos este fondo como usted bien ha señalado

llegar a acordar una enmienda transaccional nosotros queremos mucho más completa lo que está recogido dentro de nuestra enmienda a la totalidad y por tanto
nosotros vamos a defender la misma nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

que nosotros en nuestra enmienda decíamos hablábamos de consolidar el fondo interinstitucional y no aumentar

que nosotros no estamos en contra de aumentar ese fondo interinstitucional y que

pasa por enmarcar ese fondo interinstitucional en un sistema de financiación que sea

y que para saber si hay que dotar a ese fondo interinstitucional de una mayor cantidad de dinero primeramente tendremos que

de la evaluación del primer plan estratégico que en breves fechas nosotros esperamos que esté en esta cámara

para dotar para dotar debidamente ese fondo interinstitucional luego la consolidación del fondo interinstitucional como parte del sistema de financiación

siempre siempre nos reprochan lo mismo y resulta que yo aquí he reconocido que sistema vasco de servicios sociales no está exento de problemas ni de necesidades de reforma he reconocido que el método de trabajo de la colaboración interinstitucional muchas veces bueno se alarga y es largo y tedioso

para todos he reconocido ese tipo de cosas no sé dónde se ve qué hay que hacer para que a uno no lo consideren autocomplaciente porque usted mismo ha reconocido luego

algún viraje en el tema del decreto de residencias si no le he entendido mal luego dónde está la autocomplacencia

deseable llegar a un acuerdo estoy de acuerdo pero hombre no es usted la que en mejor posición está para decirlo

la herramienta en el juego parlamentario suele ser la presentación de enmiendas y ustedes no lo han hecho nosotros

pero en este juego parlamentario cuando cuando uno presenta la enmienda la presenta para marcar su posición es evidente pero también es el punto de partida a partir del cual se negocia

con el visto bueno y con la aceptación del propio gobierno el programa de gobierno y resulta que esto pues bueno se consideraba vaya usted a saber autocomplaciente

luego hay una cosa que me ha dejado bueno dice que van a votar ustedes

porque lo nuestro es cumplir la ley hombre y con la abstención qué se hace se deja la ley de lado o bueno si hay que cumplir la ley si es por cumplir la ley voten ustedes a favor

esan dio erkoreka jaunari que va a ser el único que va a oír la aportación constructiva yo nunca he puesto en duda ni el deseo constructivo de nadie

nobleza en ningún tipo de iniciativa nunca jamás

pues no son las suyas herritarrengandik urrun omen gaude

bueno no me voy a reiterar sobre aspectos que ya hemos comentado de porcentajes

y de bueno y de objetivos que deben reevaluarse y que deben

a una coyuntura determinada estoy de acuerdo

del gobierno o quizás es que hay un liderazgo un tanto interesado

en cuanto a las propuestas que ha lanzado

aceptamos escuchamos aceptamos todos esos compromisos que se comprometen a llevar adelante y

ese que ha dicho de que la evaluación estaría para finales de este año y vuelvo a decir lo mismo de antes o sea ojalá no tengamos que remitirnos a la hemeroteca para

para el nuevo plan se cuente con el tercer sector al señor urrutia bueno no sé por dónde empezar pero en principio yo creo que el voto en blanco tiene una connotación política el voto en blanco la abstención tiene una connotación política importante y yo creo que ha quedado claro en mi intervención al inicio por qué nos abstenemos porque realmente

traerlas a esta cámara es un debate que no tiene fin o sea cuando

en forma y tiempo no se han presentado entonces estar aquí hablando otra vez y diciendo por qué no estamos avanzando con el sistema de servicios sociales porque no lo hemos evaluado podemos decir que es mejor que el del estado

si no lo hemos evaluado si no tenemos los resultados de esas evaluaciones cómo podemos estar diciendo esto que funciona razonablemente bien

es que si no hay una evaluación qué pasos vamos a dar hacia adelante hacia atrás hacia un lado o hacia otro para mejorarlo y bueno

que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas

yo solamente quiero decirles

y centrado en la atención integral a las personas y llegamos al mismo acuerdo al que se llegó cuando se constituyó el primer plan o mal vamos eskerrik asko

andrea lehendakaria sailburuok egun on berriro la violencia contra las mujeres como todos sabemos es una de las

más graves más devastadoras más persistentes y más extendidas por todo el mundo afecta a todas las mujeres sin distinción a las mujeres

de cualquier lugar del mundo de cualquier clase social es una de las peores violencias además porque afecta al núcleo más íntimo de las mujeres y además en la mayoría de las ocasiones desgraciadamente esta violencia

y además a veces también esta violencia contra las mujeres afecta no solo a las mujeres también sino a sus propios hijos e hijas que conviven también en el entorno

la violencia de género por lo tanto es una realidad social que está ahí que persiste en nuestra sociedad a pesar de las diferentes actuaciones que se impulsan desde las distintas administraciones públicas y requiere sin duda un esfuerzo colectivo un esfuerzo colectivo importante e incumbe a todas las administraciones públicas y obviamente al gobierno vasco la prioridad es

salir de esta situación de esa situación de ese infierno no solo dándoles protección apoyo sino también apoyarles en las labores o impulsar mejor dicho labores de prevención

la educación impulsar una educación en valores en definitiva hay que apoyar a estas mujeres no solo

medidas concretas de protección e incidir en cuestiones que tienen que ver con la sensibilización prevención y con una educación en valores en el respeto en la convivencia y en el respeto al desarrollo personal e individual la ley del dos mil cinco para la igualdad de mujeres y hombres

lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres el gobierno vasco la pasada legislatura en su calendario legislativo se comprometió a remitir el proyecto de ley para la reeducación de la violencia contra las mujeres para el tercer cuatrimestre de dos mil dieciocho

que se debatieron en esta cámara para muchas de ellas impulsadas por el partido popular

en relación a que el gobierno vasco cumpliera su compromiso concreto de remitir este proyecto de ley yo tuve ocasión también de preguntarle al lehendakari

de su compromiso que nunca lo hemos puesto en duda señor lehendakari sí tenemos que decir que lamentamos

contra las mujeres sino que se decidió y nosotros respetamos esa decisión por parte del gobierno vasco

y por lo tanto con la disolución de la cámara no se dio oportunidad en la tramitación del mismo en este parlamento

considerado oportuno presentar esta nueva iniciativa e instar al gobierno vasco a remitir a la mayor brevedad posible el proyecto de ley

de modificación de la ley para la igualdad de mujeres y hombres que regule la erradicación de la violencia

esperemos señor lehendakari que ahora sí después del mandato al que hacía referencia

preguntas sustanciadas en esta cámara esta vez sí se cumpla el compromiso de remitir el proyecto de ley de modificación de la ley para la igualdad

con una referencia específica y una regulación concreta de la erradicación o la violencia contra las mujeres

las enmiendas también presentadas hasta iniciativa en relación con podemos pues lamentamos que no se haya sumado al acuerdo

a la remisión de dicho proyecto de ley pero sí que ustedes hablan de activar un proceso participativo que nosotros desde el grupo popular

se ha finiquitado obviamente se finiquitó cuando ya el gobierno vasco ya aprobó en consejo de gobierno un proyecto de ley de modificación de la ley para la igualdad por lo tanto creemos que esa fase está ya más que sobrepasada y luego ustedes hablan de cumplir cuestiones presupuestarias que entiendo que les incumben

por tanto tampoco hemos entendido porqué ustedes también

a esta iniciativa o en su enmienda a la totalidad cuando era una iniciativa muy concreta en relación a la enmienda de vox bueno creo que es el discurso que ustedes están realizando a nivel nacional pero

a la portavoz de vox señalándole que del grupo mixto que

estar en contra de que el gobierno cumpla un compromiso se quedó sin realizar la pasada legislatura y que obviamente creo que es importante que tengamos una nueva regulación para atajar el problema

al grupo y al partido socialista también su disposición a la señora sánchez y a la portavoz del partido nacionalista su disponibilidad a la hora eskerrik asko

como la mujer asesinada ayer en palma víctima de la violencia machista como las treinta y nueve mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en dos mil veinte en todo el estado

en todo el estado desde dos mil tres me gustaría mandar desde aquí un abrazo

redes de apoyo y además decir que todo lo que nos queda por delante por hacer y por gritar para que esto no se vuelva a repetir

doakigulako contamos con diagnósticos claros de dónde están los fallos en el sistema para no haber conseguido ni llegar a tiempo

este siglo avanza y la igualdad efectiva de las mujeres en nuestra sociedad es un reto que no puede esperar más en los últimos años

ha tomado un impulso sin precedentes consiguiendo poner la vida en el centro de las prioridades políticas y demostrando que euskadi merece construirse

por dónde tenemos que ir y qué debemos recoger en las políticas públicas que proponemos desde aquí

desde elkarrekin podemos llevamos cuatro años trabajando con esta misma determinación para poner también a las instituciones vascas a la altura de los tiempos y del movimiento que nos sostiene pero todavía hay muchísimo trabajo por hacer y no podemos esperar ya nos pasamos esperando toda la legislatura pasada

al anteproyecto de ley que aún no ha llegado cuando ahora lo que nos toca es reforzar lo que hay impulsar acciones directas que incluso con la ley actual servirían para ampliar y mejorar la atención a las víctimas de violencias machistas

que parezca que está instaurada una dinámica como la vista en el punto anterior que afecta de nuevo al impulso y control de las políticas que corresponden al departamento de la consejera artolazabal

en concreto a que haga algo que debería ya haber hecho conforme a los programas de gobiernos de legislaturas anteriores y es secundado desde los partidos que conforman el gobierno

sentarse a esperar a que los acuerdos se cumplan solos nos han echado en la cara en esta cámara que no estamos contentas con los anuncios de las medidas y trabajos que el programa de gobierno contiene

trajesen aquí el anteproyecto de ley sobre el que poder trabajar mañana mismo y nos alegraríamos más aún

si su debate se ve complementado con un debate en paralelo

para el abordaje de las violencias machistas con lo que no estamos contentas es con lo de quedarnos a esperar necesitamos prevención

sufren las violencias igual necesitamos reparación efectiva de la violencia vivida necesitamos memoria

que es necesario construir nuestra memoria social desde el feminismo

y que para ello es necesario el trabajo conjunto con mujeres y colectivos pandemia ez da amaitu

baina pandemian gutxiago y no lo digo yo lo dice el informe la igualdad en tiempos de pandemia de emakunde a puertas de otro posible confinamiento en la web de emakunde también dice que una de las prioridades en este contexto es garantizar el funcionamiento de los servicios de atención para los casos de violencia machista contra las mujeres y el acceso a dichos servicios de todas las víctimas

pero porque siempre deberían de haber sido una prioridad sin duda hay que garantizar el funcionamiento de los servicios y en este sentido hay que reconocer el gran trabajo que están haciendo las asociaciones de mujeres y supervivientes a violencias machistas a las profesionales de los ayuntamientos diputaciones policías gobierno vasco para garantizar el funcionamiento en estas circunstancias especiales pero también hay que reconocer a las redes de apoyo y solidaridad que se han creado en barrios

para que el confinamiento no suponga un aislamiento social de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad con la desescalada y según datos de emakunde en septiembre se había registrado un incremento de un tres coma cinco por ciento en las denuncias doscientos diez mujeres más que en el periodo anterior

también esto se avala desde la macroencuesta desarrollada desde el ministerio de igualdad

de verdad es suficiente con quedarnos a esperar a que llegue un nuevo

de verdad no podemos trabajar desde ya mismo por garantizar el funcionamiento de los servicios de atención para los casos de violencia machista la lucha contra las violencias machistas necesita

un avance en la garantía de derechos para las mujeres y esto solo se hace desde políticas que aborden la violencia machista como una violencia estructural

con recursos suficientes con compromisos reales porque lo quieran admitir o no es necesario superar el continuismo

de recursos hay que doblar esfuerzos hay que tener más recursos residenciales más medidas económicas que nos garanticen

la ausencia de medios económicos también es violencia queremos una seguridad humana

punitivista nos proponen que nos limitemos a cumplir acuerdos que no hacían referencia a compromiso presupuestario acuerdos tenemos y muchos

pero excusas también no señorías la pandemia no es la excusa para no abordar la violencia machista de hecho la pandemia

para reforzar y abordarla mejor más eficazmente y urgentemente y las cifras hablan por sí solas treinta mujeres asesinadas en diez años treinta cada día quince mujeres son agredidas quince al año suponen

agredidas por sus parejas ochocientos noventa y nueve

edo laguntza zerbitzuetara joan por eso la propuesta original originaria del grupo popular

que trate de conseguir avances en líneas de acción concretas y que incluye compromisos presupuestarios que ya teníamos con independencia de que luego se pudiera mejorar porque quedarnos a esperar a que llegue el proyecto de la reforma de ley nos parece que es quedarnos cortas nuestra enmienda era clara en ese sentido

mencionar todos los puntos con la enmienda transaccional a la que han llegado y con la excusa de la pandemia parece que está

que no hay garantías suficientes de que estos acuerdos se vayan a cumplir

como que también impulsarán estas medidas pero eso a lo mejor y ver venir pero nuestro temor es que no va a ser así y que no va a ser así porque esta situación

estábamos reconociendo que no se había cumplido con los acuerdos en materia de violencias machistas de gran parte de la legislatura anterior

recordar el anuncio del aumento del presupuesto que hizo la consejera en la comparecencia de la comisión y digo anuncio de forma intencionada porque bueno lanzamos al menos una petición que si la igualdad de mujeres se asume como una prioridad de este gobierno

y los treinta millónes signifiquen un anuncio que no se ha traducido ni en un refuerzo de lo que ya existía ni en avance hacia una mejora nos gustaría terminar recordando que no vamos

por que se mejore la protección y prevención de las violencias machistas y muy a su pesar la prioridad en la agenda a la lucha contra las violencias se está consiguiendo gracias

marcos teóricos las propuestas de atención las alternativas de reparación y está también denunciando el sesgo patriarcal de la justicia cuando se juzgan estos casos

buenos días en vox estamos convencidos de que la violencia

creemos que es una ley ideológica que no busca ayudar a la mujer sino fomentar una falsa guerra de sexos que en nada ayuda ni a las mujeres víctimas de malos tratos ni al resto de víctimas con independencia de su sexo se nos llena a todos la boca

todos defendemos a la mujer maltratada desde diferentes prismas pero señores renuncien al pensamiento único la esencia de nuestra sociedad se basa en la pluralidad muchos de ustedes desean acabar con la diversidad de ideologías que conviven en democracia y da fe de ello el gran esfuerzo que realizan en demonizar a aquellos que no pensamos del mismo modo nos insultan y nos

ustedes están politizando con el maltrato a las mujeres algo absolutamente indigno utilizan a las mujeres víctimas de malos tratos en beneficio político propio

social y curiosamente cada día son más las mujeres que lo sufren no se han preguntado por qué saquemos algunas conclusiones de las partidas presupuestarias cuánto dinero llega realmente a las víctimas apenas un ínfimo porcentaje

maltratadores y asesinos cumplen penas ridículas lo que hace imposible cortar de raíz la situación violenta

del débil que según ustedes debe realizar la izquierda pero qué ocurre con otros colectivos dentro del hogar como niños ancianos

qué tipo de violencia es una mujer que mata a su pareja del mismo sexo qué tipo de violencia es

efectivamente señores parlamentarios la violencia no tiene género súmense a vox y condenen todo tipo de violencia erradiquemos las violencias en el hogar

ese es el camino he vivido muy de cerca un caso de esta naturaleza y se lo puedo confirmar la sensación de abandono es total total y doloroso

una mujer maltratada cualquier víctima de violencia intrafamiliar necesita una garantía de seguridad que el maltratador no salga de la cárcel necesita tranquilidad que sus hijos

necesita soporte ayudas económicas que le permitan rehacer su vida sin dependencias en conclusión necesita un plan integral para poder rehacer su vida la ley debe garantizar la igualdad el estado debe procurar proteger al más débil con independencia de si es hombre o mujer el canalla maltratador

lejos de haber un sistema de protección efectivo tenemos un conjunto de individuos que gastan los recursos que harían posible una protección eficaz de las víctimas

en base a fundamentos como empoderar que no soportan el menor análisis científico han cosificado a las mujeres maltratadas como si de un producto con unas circunstancias idénticas y similares se tratase y no es verdad muchas mujeres maltratadas me han confesado mucha asistencia social mucho papeleo

esto tristemente es una realidad basta ya el dinero debe recaer en las víctimas para dotarlas de recursos

en una sociedad democrática hay que condenar y subsanar cualquier tipo de violencia y para terminar no hay violencia de género hay todo género de violencia muchas gracias

una iniciativa donde se solicita se remite a la mayor brevedad posible al parlamento vasco el proyecto de ley de modificación de la ley

de género es importante señalar que ese compromiso ha sido asumido en idénticos términos por el gobierno vasco tanto en el acuerdo de gobierno firmado entre el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista como en la comparecencia de la consejera de igualdad justicia y políticas sociales

no sería necesaria esta iniciativa para que quede plasmado ese compromiso asumido por el gobierno vasco ante este parlamento vasco en la presentación de los objetivos de la legislatura la consejera

que la igualdad es un objetivo prioritario del país por lo que se comprometió a propiciar un pacto de país en favor de la igualdad

de violencia contra las mujeres y manifestó su confianza en que este parlamento

la modificación de la ley vasca de igualdad entre

la actual ley se aprobó hace quince años esta ley de igualdad fue considerada pionera e incluso por su implementación recibió

el primer premio al servicio público por naciones unidas pero a pesar de ello queremos modificarla por la necesidad de reforzar las políticas de igualdad y el trabajo para la erradicación de la violencia machista adaptándonos a las nuevas necesidades y retos derivados del nuevo contexto social y avances contemplados tanto en el convenio de estambul como en la agenda dos mil treinta de naciones unidas o el pacto de estado contra la violencia de género

retos de nuestra ley es garantizar una visión sobre la ubicación de la violencia contra las mujeres dentro del problema sistémico y universal de la desigualdad de mujeres y hombres tal como señala el convenio de estambul y se comprometió actualizar

para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia machista la nueva legislación establecerá la necesidad de adaptar la respuesta interinstitucional

que tienen todas las víctimas a una atención integral gratuita accesible de calidad hacer efectiva esta nueva ley señaló la consejera va a ser eso una de las prioridades del departamento de igualdad

sociales y por supuesto del instituto vasco de la mujer emakunde y no puede ser de otra manera porque si hablamos de violencia de género

humanos un problema estructural multidimensional en cuya base está la falta de igualdad el compromiso es claro y se expuso de forma extensa desde luego rechazamos

presentado ante esta iniciativa provenientes del grupo mixto de vox que dice

que está en contra de la violencia de género para luego pedir que se derogue la ley de violencia de género porque consideran que esta ley conlleva

me recuerdan ustedes también a los negacionistas de la pandemia hay víctimas hay ciudadanos en las uci mueren personas pero hay negacionistas que están provocando

igual no ven que la ley de violencia de género lo que hace es proteger a las mujeres que son las que sufren la violencia de género y las que padecen esa desigualdad en sus casas e incluso son asesinadas por sus maltratadores y de paso

que ayudan a las víctimas y así consideran probablemente más solas en su protección después de este planteamiento decir que defienden la protección de las víctimas de violencia de género suena más o menos como un chiste por otra parte el grupo elkarrekin podemos en su enmienda a la totalidad pide dos cosas que se remita el proyecto de ley de modificación de la ley cuatro barra dos mil ocho a la mayor brevedad posible pero pide que antes se realice proceso participativo pero es que ese proceso participativo no hay que olvidar que ya está realizado es que precisamente es una de las causas por las que

del proyecto de ley de igualdad a este parlamento vasco es que se elaboró ese proceso participativo de una forma bastante amplia y además otra de las causas que retrasaron

de esa ley fue el debate entre si teníamos que tener en una única ley la ley de igualdad con lo referente a la violencia de género o

y precisamente por esta participación que se dio se llegó a la conclusión de que se quería mejor una única ley donde se recogieran

ese proceso participativo es que ya se ha realizado y

otra vez lo único que hace es retrasar en el tiempo la venida de una vez del proyecto de ley de igualdad que es lo que queremos que quedó ahí

y que lo que queremos es que venga lo antes posible y que se pueda iniciar

que se abre un periodo de comparecencias vuelves otra vez a escuchar

ya tendremos ahí esa participación es que la otra participación que pide usted ya está realizada y en estos momentos

yo creo que es innecesaria luego también el grupo elkarrekin podemos

medidas que realizaron en el acuerdo de presupuestos pero hombre todavía quedan por un lado quedan todavía dos meses para que finalice todavía el año y todavía podrán en estos dos meses efectuarse

de medidas y por otro lado digo de acuerdos y por otro lado ustedes tienen medios para poder solicitar también información sobre el cumplimiento de las mismas al grupo eh bildu pues no ha presentado enmienda entonces

voten a favor de nuestra enmienda porque recoge este compromiso asumido para traer a este parlamento a la mayor brevedad posible el proyecto de ley señalado la violencia de género no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser

consolidar eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción es una obligación nuestro grupo parlamentario está siempre comprometido en trabajar en la plena igualdad entre y mujeres y no aceptará nunca planteamientos que lejos de avanzar quieran hacernos retroceder es por ello por lo que es un compromiso asumido ya por el gobierno hemos hecho un esfuerzo en intentar llegar a una enmienda transaccional con el grupo popular

parlamento vasco inste al gobierno vasco a remitir a la mayor brevedad posible ese proyecto

atzera begiratzea lehenik eta behin eta beraz nondik abiatzen gara de dónde partimos el primer paso en el proceso que inició

y retos a los que se enfrenta nuestro país con relación a la violencia contra las mujeres de cara a una intervención legislativa en nuestro marco fue el de visualizar de dónde partíamos y en ese sentido hay que señalar que euskadi cuenta con buenos cimientos para realizar

en el desarrollo de políticas de igualdad incluidas las relativas a la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y prueba de ello es que dichas políticas son consideradas buenas prácticas y suscitan interés tanto de organismos

países y regiones estas políticas se han sustentado en un marco sólido aquí nadie se queda a esperar a que venga lo nuevo aquí no empezamos de cero llevamos un largo recorrido ya

la ley de igualdad del dos mil cinco además de ser una ley galardonada por las naciones unidas fue una ley pionera

en el marco de las políticas de igualdad tal y como he dicho al comienzo de mi intervención y esto supuso un acierto y se ha convertido además en seña de identidad de nuestras políticas de igualdad

para víctimas y supervivientes de violencia sanitarios policiales jurídicos psicosociales económicos de acogida laborales de vivienda recursos ofrecidos por ayuntamientos por las diputaciones por el gobierno en función de la distribución competencial coordinación

en más de una década se han desarrollado dos acuerdos interinstitucionales para la mejora de la atención a las mujeres víctimas

y en dos mil diecinueve permitiendo establecer mecanismos de coordinación estables

y profesionales concernidos además desde que se prueba nuestra ley de igualdad

la elaboración de protocolos locales en materia de atención de mujeres víctimas por tanto no partimos de cero no estamos esperando a que nada nos llueva del cielo llevamos trabajando mucho

firme se debe seguir avanzando adecuando constantemente las leyes los servicios y protocolos establecidos eta beraz zer egin behar dugu orain etorkizunari

unea da la igualdad es un objetivo prioritario de país y consecuentes con este objetivo se va a propiciar un pacto de país a favor de la igualdad y de una vida libre de violencia contra las mujeres ya lo decía la sailburu

que nos comentaba durante su pasada comparecencia tengo poco tiempo y por tanto aquí no me voy a extender pero bueno

para garantizar una visión sobre la ubicación de la violencia contra las mujeres dentro del problema sistemático y universal de la desigualdad de mujeres

por tanto hacer efectiva esta nueva ley va a ser una de las prioridades de este gobierno de mi grupo euzko abertzaleak del grupo

y estoy segura que de todos los grupos políticos que conformamos este arco

desde luego subrayo el compromiso del departamento de igualdad derechos humanos y justicia por poner en marcha esta legislatura por ejemplo el observatorio de igualdad de mujeres

para dirigirme especialmente la portavoz de vox y a la portavoz de podemos yo creo que el objetivo de la iniciativa era muy concreto era la remisión del proyecto de ley que está pendiente desde el tercer cuatrimestre del dos mil dieciocho yo creo que

que obviamente si hay una regulación pendiente pues puedan caber iniciativas pudiendo

pendientes cuanto antes efectivamente hay distintos tipos de violencia condena todas las violencias pero en este caso estamos hablando

de género yo en mi intervención también he hecho referencia a la violencia que se puede sufrir en el entorno familiar coma a veces también la violencia de género afecta a los propios niños

de la familia y en este sentido usted sabe como yo sé que el gobierno de mariano rajoy hizo una modificación específica para tener en cuenta precisamente a los niños que sufren esa violencia para concederles también las ayudas correspondientes por lo tanto

hacia las consecuencias de la violencia que se sufren en el entorno familiar derivada de la violencia de género

ha sido claro decía la portavoz de podemos

del gobierno de remitir ese proyecto de ley a mí me parece que hoy

y esperemos que esta vez sí se cumpla porque creemos que ese proyecto

y que obviamente lo tengamos en esta cámara en la medida de lo posible lo más pronto posible está la consejera artolazabal y creo

en esa línea y cuando se remita pues lo estudiaremos lo analizaremos y cada grupo tendrá la posibilidad de enmendarlo en el sentido que corresponda que

que se hizo un proceso participativo pero también es verdad que fue muy cuestionado sobre todo por la parte

nos parece que ahora la coyuntura es distinta y que es verdad que se deberían hacer algunas aportaciones cuando menos nuevas no en cuanto a lo de las solicitudes de información pues

compromisos de los compromisos presupuestarios a los que se llegaron y que hay una falta pongo dos ejemplos la elaboración del plan de formación en igualdad y vidas libres de violencias machistas

o el otro que era el incremento de la dotación presupuestaria destinada a actividades relacionadas con la comisión de seguimiento del segundo acuerdo institucional nosotras hemos

la ejecución de las partidas y no aparece gasto alguno ejecutado ni previsión de gasto si lo van a hacer en estos dos últimos meses que quedan pues bueno ya estaremos

pobre la gente que tenga que recibir esa formación hablamos de compromisos eso que están avalados

tampoco se ha ampliado el servicio zurekin como se había prometido

el aumento del presupuesto anunciado a la señora martínez

varias cositas por un lado niega la violencia contra las mujeres como violencia estructural y con el señalamiento que hacen de las feministas

yo creo que están siendo el ejemplo práctico y perfecto de la violencia que niegan por otro lado dicen preocuparse por la atención a las mujeres que sufren violencia pero no tienen propuestas niegan su relato y votan en contra del despliegue de medidas para su protección mire venimos de una lucha histórica que va sumando hitos y encuentros como el que he mencionado de durango donde nos interpelaban a trabajar

y a esta cámara venimos a construir políticas públicas no a bloquear intentos de construirlas venimos

donde mujeres como clara campoamor nos facilitaron la materialización del sufragio como las once de basauri que sacaron el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos

o mujeres como ángela davis o silvia federici

que han ido desgranando y construyendo esta casa común que es un movimiento feminista plural

de las opresiones que vienen marcadas por la clase la raza la colonialidad y su impacto en las vidas y cuerpos de todas nosotras venimos de todas ellas y sabe que tienen en común que todas en algún momento han sido declaradas enemigas del estado nación

de ser traidoras por todas ellas está usted hoy aquí con derecho a voz y voto por todas ellas que usted forma parte de esta cámara como lo formamos el resto de mujeres feministas y parlamentarias que nos encontramos aquí y bueno yo creo que es el momento de dejarse de inventar enemigos que no son reales

porque nos avalan siglos de lucha y porque vamos a seguir aquí presentes y somos y seremos imparables

intrafamiliar no por ello vamos a decir que no queremos la defensa de las mujeres maltratadas lo digo alto y claro para que quede ya constado por supuesto que vamos a seguir defendiendo a las mujeres maltratadas pero queremos que también se incluya a otros sectores

para nosotros es un chiste no contemplar que existe la violencia intrafamiliar creemos que hay que educar en que no debe existir en nuestra sociedad ningún tipo de violencia

estamos también totalmente de acuerdo en que hay que acabar con la violencia de las mujeres vuelvo a repetirlo y además lo he dejado claro en mi intervención pero lo que no puedo es apoyar un principio de ley en el cual la violencia de género parte de un principio falso los hombres maltratan y matan a las mujeres en tanto en cuanto son hombres esto para nosotras es inadmisible

generalizar en todos creemos que hay que estudiar mucho más esto que están diciendo muchas gracias eskerrik asko martínez andrea euskal sozialistak

estamos satisfechos de que hemos llegado a una enmienda transaccional aunque ya he indicado

era un compromiso que ya lo teníamos asumido tanto en el acuerdo

como por parte de la señora artolazabal se expuso aquí en su comparecencia en el parlamento pero señora garrido es curioso que usted no haya entrado en el fondo de la enmienda a la totalidad

que ha presentado a esta iniciativa el grupo de vox y aunque me alegro de la enmienda transaccional a la que hemos llegado

sinceramente me preocupa que hoy está en las redes por ejemplo distintas informaciones sobre la política que se está realizando por ejemplo

por su grupo por el grupo popular y ciudadanos dentro del gobierno de andalucía y que viene a reproducir precisamente

a la totalidad el grupo de vox ustedes han dejado en andalucía doscientos cuarenta y uno proyectos feministas sin financiación

y dice la señora martínez no es que yo quiero que se les quiten las ayudas a las asociaciones

pero a continuación he leído también esta misma mañana se ha aprobado cero euros para pisos a mujeres maltratadas en andalucía dos millónes para toros hombre no sé se lo quitan a las asociaciones

maltratadas y luego por otro lado he leído otro artículo

y la pandemia provocan recortes de las políticas feministas en andalucía

intrafamiliar les suena el discurso que hemos oído esta mañana con la política que han es que lo he leído esta mañana son todo esto noticias de hoy y eso sinceramente me causa pena que ustedes estén aplicando

en otras comunidades autónomas donde ustedes gobiernan lo que precisamente les están exigiendo desde el grupo

y señora gonzález hemos intentado llegar a un acuerdo transaccional con usted en el primer punto estamos completamente de acuerdo ustedes tenían que la ley el proyecto de ley venga a este parlamento en la mayor brevedad

yo creo que esa participación se dio pero es que además como he indicado en mi primera intervención cuando

otra participación y ustedes tienen la posibilidad de solicitar las comparecencias

antes de que los diferentes grupos parlamentarios elaboremos nuestras enmiendas

a la mayor brevedad posible lo lógico es que venga lo antes posible

esas peticiones de comparecencias aquí y luego los diferentes grupos ya

las aportaciones que consideremos pertinentes y por nuestra parte nada más desde luego simplemente pues en el día de hoy

pero me gustaría que lo que aquí se exige por algunos grupos también se aplicara en las comunidades autónomas

junto a sus maridos que han muerto a esas brujas que quemaron por el simple hecho de ser mujeres